gracias señora presidenta señora presidenta miembros de la mesa

hemos presentado a la consideración de la mesa y de este pleno la toma en consideración de una

de modificación del tribunal vasco de cuentas públicas en la anterior legislatura también se plantearon sendas propuestas de modificación de

del tribunal vasco de cuentas públicas y la propuesta que presentamos nosotros hoy aquí para su toma en consideración en parte asume también todos los trabajos que realizó la ponencia anterior

alguna de las enmiendas que otros grupos plantearon en aquella intervención en aquella ponencia porque creíamos que está a favor

de este órgano tan importante en la gestión de los asuntos públicos y concretamente de las finanzas

el tribunal vasco de cuentas públicas es un órgano ciertamente de una capital importancia en tanto que como órgano externo de control

de evaluación crítica de la gestión pública efectuada desde una perspectiva técnica y objetiva el tribunal vasco de cuentas públicas

al poder ejecutivo este ejercicio de la función fiscalizadora debe reforzar siempre la transparencia y la rendición de cuentas al conjunto de los ciudadanos contribuyendo de esta forma así a una mejor adopción de medidas por el propio órgano y sobre todo a una mejor adopción de medidas por parte del propio parlamento y del propio

miren tres son los criterios fundamentales que informan esta proposición de ley que les presentamos aquí tres criterios el primero el criterio de la independencia

y el tercero el de la transparencia en cuanto al primer criterio quizá lo más importante de ello es que este tipo de órganos de control que existen

externos de control además del tribunal de cuentas nacional es necesario en nuestra opinión y es algo consolidado no solamente

perdón decía que es importante tener en cuenta que

la necesidad de la autonomía la independencia y la imparcialidad de estos órganos hacen hincapié en una serie de elementos que nosotros hemos recogido en nuestra proposición concretamente es muy importante siempre cualquier tipo de sombra de duda sobre vínculos o posibilidades de control por parte de los partidos políticos o de otras fuerzas de poder

de cuentas en este caso el tribunal vasco de cuentas públicas son muchas las opciones para establecer un organismo un elemento de control sobre las finanzas públicas hay países en los que se ha designado tradicionalmente una sola persona el caso prototípico es por ejemplo chile

a su cargo hay otros países por ejemplo en europa se suele emplear también

siempre a través de un procedimiento que garantice la máxima imparcialidad con lo que se llaman lo que se llaman comparecencias de los posibles candidatos y recurriendo siempre a mayorías muy cualificadas todo ello en un proceso que sea transparente no solamente tiene que ser transparente

por eso nosotros hemos planteado esta propuesta que incluye esencialmente tres en primer lugar lo que hemos planteado lo que se plantea es modificar los requisitos para ser elegible como miembro del tribunal vasco de cuentas públicas se regula específicamente la duración del mandato con la finalidad de evitar

y preservar de esta manera su independencia imparcialidad y objetividad

es feo como poco es feo al margen de las competencias que puedan tener las personas que son designadas para este tipo de cargos que vengan sean personas que vengan de ser inmediatamente parlamentarios miembros de un consejo de gobierno autonómico

o miembros de una diputación foral o del gobierno de una diputación foral como poco es algo que resulta feo por eso entendemos que es muy conveniente mandar un mensaje claro a la ciudadanía para garantizar realmente la independencia y la imparcialidad en segundo lugar se plantea también una mayoría cualificada el aumento mejor dicho de la mayoría cualificada designación de los miembros del organismo que pasaría de la mayoría absoluta a los tres quintos además se establece también

y lo que pretende esta propuesta es que el tribunal vasco de cuentas públicas asuma también el control de la actividad económico financiera

e incluso que se aumente el control sobre las asociaciones y fundaciones que están vinculadas a partidos políticos finalmente finalmente la propuesta también intenta introducir y sobre todo creemos que lo hace de manera satisfactoria

de la publicidad de la transparencia tan importante en la gestión hoy día de la cosa pública por eso señorías planteamos nosotros hoy ante este pleno

para la toma en consideración de esta proposición de ley de modificación del tribunal vasco de cuentas públicas para colocarlo de nuevo en un lugar que nunca ha debido de abandonar ningún tipo de órgano de control sobre las cuentas públicas que es el de la máxima independencia el de la máxima imparcialidad y

en el caso del señor bilbao con la carta de presentación de su discurso de despedida es un añadido más pero me parece importante tenerlo en cuenta y en consideración y decía lo siguiente a los ausentes y a los presentes pueden estar tranquilos porque nunca mis memorias memorias en las que podrían aparecer personas con sus grandezas y con sus miserias he visto a personas pagando con fajos de billetes sin demostrar su origen y que ha visto repatriar dinero de origen desconocido

pero independientemente de esto que tiene su gravedad cómo es posible como decía en euskera que siendo el responsable

entes y empresas públicas cómo es posible que pase de la noche a la mañana a ser el presidente de un tribunal que tiene que fiscalizar y controlar

y los pagos de dicha institución pues simplemente es posible porque la ley lo permite pero que la ley lo permita no significa que esté bien de hecho este tipo de actuaciones menoscaban la credibilidad de la propia institución nosotros y nosotras al menos así lo creemos y por eso presentamos esa proposición de ley

ahora para que no se vuelva a repetir la historia porque el año que viene seguramente en el primer semestre de este dos mil veintiuno

se agota el mandato de sus miembros y se procederá a la renovación del tribunal vasco de cuentas públicas por lo tanto

por lo menos desde nuestro grupo que con cierta celeridad se debe crear esta ponencia para que no se vuelva a repetir lo que ocurrió ya hace cinco años y que podamos llegar a tiempo para que ese nuevo nombramiento de las personas que compongan el nuevo tribunal vasco de cuentas públicas en base a otros criterios y además y creemos y lo décimos con honestidad que hay que hacerlo de manera sincera con una perspectiva amplia y con la máxima transparencia y objetividad desde el parlamento sí y con control parlamentario también pero alejado de los intereses partidistas

se convierta en un cambio de cromos un intercambio de puestos para unos y para otros

cómo se hizo la otra vez este nombramiento negociamos por aquí quien va a ser el ararteko y quién es su adjunta

en el tribunal vasco de cuentas públicas para ti la presidencia pero a mí que me corresponde uno le quitamos uno a eh bildu y me das dos

metemos en el pack el nombramiento de la directora general de e i te be por favor por favor estas cosas

ez dago erreplikarik kontrako txandan alguien quería intervenir en el turno en contra no

hay un turno a favor y un turno en contra si el turno en contra no participa no hay
turno de réplica eh es así bueno como usted diga

porque nos vamos a posicionar sobre la iniciativa de eh bildu bale zuek ere bai

martínez andrearekin mistoarekin hasiko gara hola buenos días a todos

uno barra mil novecientos ochenta y ocho de cinco de febrero del tribunal vasco de cuentas públicas nuestro criterio ha sido votar en contra de la iniciativa de eh bildu y la explicación es la siguiente

que quieren incluir del artículo quince punto dos en el que no se establece

con lo que se entiende que lo dejarían en mayoría simple ahora esa absoluta entendemos que esto es un retroceso en la búsqueda de consensos amplios para la designación de los miembros del tribunal

asociaciones y fundaciones vinculadas a partidos políticos la apuesta por la transparencia un plazo de cuatro meses para analizar la liquidación de los presupuestos de la comunidad autónoma

para los miembros que deberían ocupar las plazas del tribunal por ello hemos votado que sí a la de pp ciudadanos eskerrik asko martínez andrea

altxa hori da muchas gracias señora presidenta bueno brevemente

del grupo bildu porque evidentemente aunque también nosotros planteamos la modificación de esta ley lo que pasa es que la propuesta que establece el grupo eh bildu habla de en el fondo transformar el tribunal vasco de cuentas públicas prácticamente a una representación proporcional del parlamento porque dice

esa propuesta no evitaría los problemas que usted ha denunciado

con serias dudas además de posible imparcialidad pero claro si transformamos esto simplemente en un cupo para cada grupo parlamentario

nuestra propuesta va en el ámbito de fomentar la independencia la imparcialidad y muy importante sometiendo a todos los candidatos

a una estricta comparecencia en la que realmente y

bai bueno voy a ser muy breve básicamente mesedez altxatu

votado favorablemente a las dos proposiciones es porque ambos grupos

actual a los principios de independencia e imparcialidad objetiva y neutralidad

en la legislatura anterior respecto a la elección de las y los miembros y el régimen de incompatibilidades bueno habrá que ver en la tramitación exactamente cuál es la forma

bueno habrá que ver cuál es la mejor fórmula o si existen otras

plantear incompatibilidades de cara a evitar posibles puertas giratorias como también se ha dicho en alguna otra intervención respecto a la duración del mandato

en nuestra consideración una cierta garantía de cara al fortalecimiento de la neutralidad política respecto a la extensión del ámbito de control que también se ha hecho mención a ello

que se extienda el control al parlamento vasco que a día de hoy básicamente la labor que realiza el tribunal es de asistencia y no tanto de control y fiscalización del parlamento vasco respecto a sus finanzas y también que se extienda a las asociaciones y fundaciones vinculadas a partidos políticos

en relación con el tribunal vasco de cuentas públicas figure en el portal de transparencia y en ese sentido pues consideramos adecuado que se vuelva a trabajar y también como se ha mencionado

en el primer semestre del año que viene no nos encontremos sin esto por concluir eskerrik asko eskerrik asko soto jauna euskal sozialistak corcuera andrea

con su permiso desde el escaño los socialistas vascos hemos votado a favor de ambas proposiciones de ley en coherencia con el sentido también de nuestro voto

basados además en los mismos motivos que ya expusimos también en su momento

que el veintiséis de enero de dos mil diecisiete comentaba cuál era la justificación de los socialistas vascos para modificar

que regulaba el tribunal vasco de cuentas públicas abordando la reforma y la actualización de los organismos que dependen del parlamento y que rinden cuentas

esperamos los socialistas vascos que con esta nueva toma en consideración el trámite parlamentario

puesto que la mayoría de los que estamos aquí ya manifestamos nuestra posición y aportaciones en forma de enmiendas

de esa ley que regula el tribunal vasco de cuentas públicas para los socialistas vascos lo importante en este asunto es mejorar el funcionamiento del órgano fiscalizador de las actividades financieras y contables del sector público vasco y por ello nuestras enmiendas y nuestras aportaciones fueron planteadas en su momento con el objeto de evitar conflictos de intereses

a las exigencias de la ciudadanía del siglo veintiuno estamos hablando del tribunal vasco de cuentas del supremo órgano fiscalizador de las actividades financieras y contables del sector público vasco y todos coincidiremos en la necesidad

reforzar las condiciones de imparcialidad de experiencia y de conocimiento técnico de sus miembros lo cual no significa exigir asepsia política todos tenemos una forma

los profesores lo que se pide a quienes tienen encomendado el servicio público de la justicia de la seguridad de la salud o de la educación es que ejerzan sus funciones

así lo dijimos los socialistas vascos en su día y seguimos convencidos de lo mismo cuatro años después la posición de los socialistas vascos es clara queremos actualizar las instituciones

que hace dos o tres décadas tenían un sentido pero que hoy tienen otro y en el parlamento vasco se han ido dando pasos para esa adaptación institucional a los nuevos tiempos en la décimo legislatura aprobamos a instancia del grupo socialista

de intereses que es muy exigente con quienes ostentan cargos públicos es una ley pensada para eliminar sospechas sobre la actividad política pero sin querer convertir

sobre el tribunal fiscalizador pero sin hacer culpables a quienes han desempeñado esa labor aquí la cuestión

eficacia quiere tener confianza en sus instituciones en la gestión en la prestación de servicios y en la atención y quieren también confiar en cómo se fiscalizan las cuentas de las distintas administraciones que esa es la función que tiene el tribunal vasco de cuentas públicas el objetivo

aquel dicho de a la tercera va la vencida esperamos que lleguemos a culminar esa ley gracias eskerrik asko corcuera andrea euzko abertzaleak berrojalbiz andrea zurea da hitza

siempre hemos defendido que la creación de este tribunal supuso hace más de treinta años un importantísimo paso adelante en el desarrollo del autogobierno de euskadi y seguimos pensando lo mismo

debe ser actualizada de ahí nuestro voto favorable pero nuestro objetivo va a ir más allá de una mera actualización de un artículo sobre el nombramiento de los y las miembros del tribunal tal y como propone eh bildu quienes se limitan a copiar su iniciativa de dos mil quince sin incorporar sus propias enmiendas del diecisiete el grupo popular ciudadanos al menos

cuál es el objetivo de eh bildu proponiendo modificar solo el artículo relativo a los y las miembros del tribunal

nuestro objetivo será actualizar la ley en su integridad para su modernización jurídica y presupuestaria

para ello tenemos esta nueva oportunidad creemos que sería deseable y será nuestro empeño en la tramitación de esta ley alcanzar acuerdos de largo recorrido por qué por el bien de un órgano que es de vital importancia para el control de las cuentas públicas y que realiza un papel esencial para el correcto funcionamiento del estado de derecho les pedimos que pongan las luces largas

y a su entender falta de confianza de quienes trabajan en este tribunal sepan que todas estas turbulencias artificiales solo dañan la imagen de un órgano que necesita otro clima

paso a comentar alguna de las modificaciones propuestas en las dos iniciativas

eh bildu propone cupos de proporcionalidad y a su vez objetividad y neutralidad de los y las miembros se pretende buscar la neutralidad y objetividad

pero por otro lado eh bildu quiere estar representado en el tribunal de cuentas en proporción a su representación en esta cámara pero de qué estamos hablando

proporcionalidad kontradikzio hutsa da siendo así dónde está el problema no está en que sean designados por el parlamento no sino más bien en la pertenencia a eaj pnv

bigarrenik ambos grupos proponen que haya una especie de cuarentena de ciertos años para acceder a cargos de este tribunal unos piden más años que otros

eres menos sospechoso por el transcurso del tiempo ser parlamentario implica ser presunción de culpabilidad partimos todos de ser sospechosos o igual eres sospechoso en función del partido político al que perteneces

en esta vía de la sospecha vuelve a concitar hoy a josé luis bilbao pero por qué tanta obsesión

designados por el tribunal constitucional tribunal de cuentas español

ustedes dudan de la competencia de estas personas berrojalbiz andrea

ella se suman las normas vinculadas al código ético que escrupulosamente deben cumplir por tanto quienes ostentan estos cargos cumplen con los requisitos requeridos no son causa de incompatibilidad alguna

hirugarrenik proposatzen da por el grupo popular se piden mayorías cualificadas para qué solicitar mayorías cualificadas podría tener más sentido donde el bipartidismo es real aquí no hay un partido con mayoría absoluta como por ejemplo sí lo hay en galicia

pero bueno ya tendremos tiempo y ocasión de analizar todas estas cuestiones con detenimiento baina hori bai mesedez

legebiltzarkideok es cierto hemos llegado

desde luego estábamos de acuerdo con la orientación que entendíamos que

eh bildu la señora ubera hemos hecho una enmienda a la totalidad algo más genérica pero con una cuestión que para nosotros es

y que es donde me parece que deberíamos ponernos de acuerdo nosotros creemos que deberíamos ponernos de acuerdo ya sobre esto

pensamos sobre todo que se trata de normalizar sí poco a poco la atención de los pacientes

individualizada pero normalizarla poco a poco no quiere decir mantenernos mantener el sistema al albur

ya se tienen que poner los medios y los mecanismos para que el sistema esté preparado para garantizar la atención ordinaria

porque la pandemia está ahí y va a estar un tiempo ahí por eso pensamos que hacerlo paulatinamente

enmienda no es esperar a poder hacerlo cuando bajen los picos de contagio cuando la pandemia lo permita pensamos que se debe actuar previamente y pensamos que aquí pues el gobierno al menos ha ido tarde osakidetza no ha puesto en marcha una adecuada planificación ni tampoco los necesarios refuerzos

con garantías a los eventuales rebrotes del virus

en uno potente y eso está teniendo consecuencias en la atención al resto de patologías a la atención ordinaria de nuestro sistema público de sanidad

me voy a abstener de utilizar la palabra porque no quiero que el debate gire en torno a términos aunque desde luego esa es la definición que nos daban ayer por ejemplo en la comisión

varios de las y los representantes de los trabajadores que están ahí

la cuestión es que en la atención y en la atención primaria está siendo imposible atender toda la actividad asistencial a eso le podemos poner el nombre que queramos hay retrasos constantes

del resto de patologías distintas al covid retrasos que pueden tener graves consecuencias para la ciudadanía como sucedió en marzo ya no se puede llegar a todo

no urgente y esto es preocupante nosotros también hemos venido diciendo que pensamos que en marzo era inevitable pero pensamos que ahora no era tan inevitable y parecida situación en todos los ámbitos asistenciales donde la carga de trabajo lo pudimos comprobar ayer también en la comisión la presión es cada vez mayor

renunciar a descansos doblar turnos algo que pensamos que no debería estar pasando si efectivamente nos hubiéramos preparado adecuadamente

a las patologías por eso pensamos que hay que combinar hay que garantizar que se combine la demanda cotidiana del día a día y la demanda ocasionada por la pandemia

pero sobre todo pensamos que es complicado si además no se ha hecho el trabajo previo de refuerzo suficiente y necesario de profesionales y sobre todo o

que será doblemente complicado en el futuro cercano si no se actúa en estos momentos de una manera contundente si no se refuerza ya con los profesionales adecuados y suficientes las funciones de la atención primaria

algo que deberíamos evitar estando de acuerdo también porque creo que hay que mencionarlo en las ventajas o aportes

a la pandemia y que con la pandemia se han incrementado y ampliado funciones creemos que los y las profesionales de medicina y enfermería de atención primaria deben desarrollar esencial la actividad asistencial presencial con el paciente y tratar de garantizar y preservar las características de la atención en el primer accesibilidad y proximidad también con la pandemia por eso décimos que lo deseable es poder hacerlo ahora poner los medios para que se puede hacer ahora y no estar exclusivamente al albur de la evolución de la pandemia no esperar a que vuelva a bajar el pico poner los medios porque también es posible que en el futuro venga un nuevo tercer pico y pensamos que tenemos que estar preparados para garantizar esa atención e incluso en esas circunstancias para ello es importante una serie de medidas

sacar de la actividad diaria de los perfiles profesionales de medicina y enfermería actividades de perfil administrativo muchas de las cuales vienen motivadas por la propia

es fundamental también contratar profesionales de perfil administrativo no solo pero también

muchas veces que hacen falta más recursos y más inversión y esto es cierto pero hoy también venimos a decir que no solo que no es suficiente con más recursos

pensamos que es necesario también fijar dónde deben desarrollar su actividad profesional y con qué orientación las y los profesionales de la sanidad pública para garantizar tanto la atención covid como la atención sanitaria de carácter ordinario esto en estos momentos no se está haciendo adecuadamente

a los grupos de población seleccionados a los contactos etcétera

pero nuestras y nuestros profesionales tienen que estar con los pacientes con los covid con los pacientes no covid con el resto de patologías el objetivo

muertes por coronavirus pero también el objetivo evitar ingresos por otras patologías el papel de la atención primaria no puede limitarse a contener la presión asistencial colaborar con los

identificación de contactos de los infectados y asumir la gran cantidad de funciones administrativas y burocráticas derivadas de la pandemia

para que las y los profesionales puedan dedicarse adecuadamente también al trabajo ordinario

las esperas para hablar por teléfono con sus médicos médicas enfermeros enfermeras las colas en la calle para acceder a determinados centros de salud sumadas a las listas de espera están generando además una situación de malestar con el personal sanitario que no es el responsable de esta situación es preocupante

explicarnos cómo habían subido los índices de agresión a profesionales en nuestro sistema esto es preocupante también

a todo esto pensamos que es importante abordar ya con determinación la integración de la atención sanitaria y los cuidados sociales especialmente de las personas mayores y los sectores más vulnerables donde está teniendo una mayor incidencia el virus desde el inicio de la pandemia

sobre todo con un aumento de profesionales de enfermería deben ocuparse de dichos cuidados tanto en residencias como en domicilios en centros y comunidades protegidos nosotros el mensaje la posición que queremos sobre todo trasladar hoy hemos llegado a un acuerdo

hubiera sido posible nosotros hemos dejado que de alguna manera lleve las negociaciones quien nos ha traído la propuesta a nosotros nos trasladaron una propuesta de transacción estaban incluidas nuestras consideraciones y por lo tanto dijimos que sí para nosotros el mensaje fundamental es que tenemos que preparar ya

para que la pandemia no suponga que dejemos la calidad y el servicio asistencial de la sanidad ordinaria para que no sufran

para nosotros ese es el mensaje es verdad que en la enmienda del grupo pnv y partido socialista hay cosas interesantes o que yo creo que podemos caminar en una misma dirección pero nosotros todavía echamos en falta o nos parece que el gobierno todavía plantea la cuestión

al albur de la evolución de la pandemia creemos que el objetivo tiene que ser que independientemente de la evolución de la pandemia tenemos que garantizar estar preparados para atender

genizkion osasun sailari como decía volvemos a hablar de atención primaria sin duda muy importante cuando hablamos de asistencia sanitaria hablar de atención primaria puesto que es la puerta de entrada al sistema sanitario y el nivel asistencial más próximo al ciudadano en este nivel en la atención primaria se abordan muchísimas cuestiones que tienen que ver con la prevención y la promoción de la salud con el diagnóstico es el

los ciudadanos cuando no tienen una atención urgente

crónicos de todo lo que tiene que ver con las patologías crónicas también consultas telefónicas que se puedan dirigir en esos bueno en determinados momentos a los profesionales de la salud a los médicos y enfermeras de atención primaria

la gestión y el impacto que ha tenido la gestión del covid diecinueve específicamente en la atención primaria que sin duda ha generado

por parte de la atención primaria y por parte de sus profesionales a los que nosotros desde luego queremos otra vez hacer un reconocimiento que también lo queremos hacer extensivo al conjunto de los profesionales de la sanidad vasca

en estos momentos han aflorado muchísimos problemas que estaban ahí en relación a la atención primaria que ya los pusimos encima de manifiesto se pusieron encima de manifiesto

la pasada legislatura cuando abordamos la estrategia de atención primaria con medidas específicas a corto medio y largo plazo nosotros en esos momentos sí que señalábamos que esta

para abordar los retos no solo que en ese momento y los problemas que presentaba la atención primaria sino retos de futuro y uno de ellos bueno pues muy evidente era la falta de profesionales

que los profesionales sanitarios tuvieran que atender a un número más mayor de pacientes que obviamente no se pudiera dar una atención adecuada

a los pacientes que acudían a la atención primaria pero dicho esto sí que entiendo que esta iniciativa es oportuna pero también entendemos

sanitaria y la situación de la situación sanitaria en su integridad y en ese sentido también porque no quisiera tampoco

que abordamos compartimentos estancos a la atención primaria y la atención hospitalaria principalmente porque si algo también nos ha enseñado la gestión del covid diecinueve es que bueno pues ambos

especialmente coordinados problemas que estaban ahí o problemas que también se han visto han aflorado con la gestión del covid hemeretzi algunos estaban ahí no los veíamos de forma tan clara pero estaban ahí

tiene que ver también con que se ha perdido y se pierde de hecho demasiado tiempo

auxiliares de enfermería también en tareas especialmente dedicadas a la burocracia es decir a la administración yo creo que

la coalición partido popular ciudadanos creemos que hay que descargar a los profesionales sanitarios

puedan ejercer las funciones sanitarias que tengan encomendadas han surgido también problemas organizativos propios de la gestión del covid y que estos problemas también

dedicado a las labores de rastreo a profesionales sanitarios con un esfuerzo importante que ha detraído recursos de la asistencia sanitaria indudablemente todos vemos que hay menos tiempo para atender a los pacientes a pesar del esfuerzo que están haciendo los profesionales sanitarios

considerablemente aumentado con lo que el tiempo de atención también ha disminuido y también las consultas telefónicas

están siendo un problema porque hay dificultad para contactar telefónicamente con los servicios de atención

de forma telefónica cuando la forma idónea para atender muchas situaciones no voy a decir todas es la consulta presencial bueno en ese sentido nosotros presentamos una enmienda

pero recoge básicamente propuestas de la iniciativa original de eh bildu

entiendo que de los grupos mejor dicho partido nacionalista vasco y partido socialista nosotros entendemos

que bueno hay algunos aspectos que pueden estar bien y en ese sentido como nos íbamos a abstener en cada una de las enmiendas

en la enmienda de transacción presentada a nosotros sí que nos hubiera parecido interesante también en la enmienda de transacción si hubiera hecho una referencia a las de atención primaria creo que más allá de que se puedan adoptar medidas en estos momentos específicas

a situaciones de urgencia que podamos tener en estos momentos en la atención primaria yo creo que también

optimistas y teniendo en cuenta que al final o el virus desaparecerá bien porque desaparecerá

una vacuna que nos permita una inmunidad respecto

protegernos de cara a este virus creo que también hay que ver una perspectiva más amplia de la atención primaria con los retos

con un enfoque de salud que tiene que incidir claramente en políticas de prevención y promoción de la salud y reforzar también todo lo que tiene que ver con la atención domiciliaria en cuanto al rastreo sí coincidimos en que es necesario reorganizar las labores de rastreo descargar a los profesionales sanitarios que puedan estar haciendo estas labores

que se están quitando de otros sitios nosotros incorporamos

una precisión importante que nos parece que también se puedan tener en cuenta las labores que en este sentido está haciendo el ejército en otros lugares de españa y que está siendo

importante algo que no se hace en la enmienda de transacción hacer una referencia también específica a lo que es la atención domiciliaria y en con concreto a los equipos del consejo sanitario y

del ciento doce por lo tanto bueno entendiendo que

por los grupos que apoyan al gobierno pueden estar bien también creemos que otros puntos pues se puedan quedar sobre todo algunos puntos

los grupos que apoyan al gobierno también se pueden quedar cortos pues bueno preferimos obviamente mantener la enmienda presentada por la coalición partido popular ciudadanos besterik gabe eskerrik asko

coincido con la señora garrido en que efectivamente no hablamos de compartimentos estancos porque evidentemente

ámbitos y ha afectado por completo también ha impactado en el ámbito sanitario como saben los datos tanto en euskadi como en el resto de nuestro

evidente en el sistema asistencial en

es importante repetirlo precisamente para ser claros y no crear expectativas

puedan crear frustración y en ese ser claros yo creo que hay que decir

instituciones que la situación epidemiológica va a seguir condicionando de una forma evidente las estrategias a desarrollar en los diferentes dispositivos

en todos los países de nuestro entorno en todas las comunidades autónomas y evidentemente euskadi no es ajena a esta situación

afecta a uci afecta a las urgencias y también afecta a la atención primaria y también en más de una ocasión lo hemos dicho aquí y lo seguiré diciendo y me lo seguirán oyendo evidentemente como decía la señora garrido

más idóneas y añado y tampoco son las más cómodas para la ciudadanía es verdad es verdad es cierto pero en la toma de esas decisiones

es precisamente garantizar la seguridad de pacientes y también de profesionales

es lo que ha hecho que para enfrentarnos a la covid diecinueve haya sido necesario reorganizar pues toda la asistencia sanitaria y lo vuelvo a decir

que se han adoptado debe decidirse al menos a nuestro juicio en base precisamente a esos mismos parámetros y por supuesto haciendo un seguimiento continuo

de la pandemia a nadie se le oculta lo dijo la propia consejera en la respuesta a la interpelación que lo que están gestionando nuestro sistema sanitarias

añado que es una realidad cambiante absolutamente cambiante y que está alterando por completo nuestras vidas y ese cambio de nuestra normalidad esa alteración de nuestra normalidad pues trae también consigo una alteración de la normalidad

una alteración también en la normalidad de la prestación de determinados servicios y pretender otra cosa es simplemente querer negar la realidad solamente hay que ver

o querer pasar por alto la situación de absoluta excepcionalidad en la que nos ha asumido esta situación de una pandemia

la configuración ordinaria de todos nuestros sistemas sanitarios vuelvo a decir

ninguna excepción no estaban ni pensados ni estructurados para que su objetivo principal fuera hacer frente a una pandemia y esto

se vengan haciendo esfuerzos por los diferentes gobiernos por los profesionales sanitarios por los ciudadanos para adoptar decisiones y para adaptarnos también decisiones y en este parlamento se ha venido dando cuenta a lo largo de diferentes intervenciones de las numerosas actuaciones que se han adoptado para hacer frente a esta

comités técnicos protocolos planes de contingencia refuerzos de plantilla adquisición de equipos formación y también en la atención primaria no se han dejado de prestar apoyos a las estructuras del servicio se nos dijo en la respuesta se ha añadido la valoración telefónica

se ha dado la diferenciación de los circuitos de asistencia

que tratar de dar la asistencia sanitaria más segura posible en cada momento

lo importante esto que se ha hecho no significa que no haya nada por hacer yo creo que esa es la declaración más importante que se puede escuchar

y en este mismo parlamento tanto por parte de la propia consejera como de los grupos

han oído en más de una ocasión que evidentemente hay un compromiso de mejora de mejora sobre lo que hemos aprendido respecto a la primera ola ahí existe un ámbito de reflexión para ver qué es lo que ha funcionado bien qué es lo que se tiene que mejorar y qué es lo que tenemos que hacer y

en ese compromiso de mejora hay una apuesta absolutamente clara por la atención primaria y por seguirla reforzando como el nivel asistencial de mayor cercanía

además tal y como se recoge en el propio acuerdo de gobierno y aquí tengo otra coincidencia con la señora garrido lo hacemos con la atención primaria para dar una solución para dar soluciones en base a lo que está planteando la covid diecinueve y también valorando el reforzamiento de la atención primaria a lo largo de la legislatura con independencia de

es donde hemos planteado nuestra enmienda partido socialista y partido nacionalista vasco

diversos puntos que yo creo que son importantes porque son compromisos que asume este gobierno

en primer lugar planteamos una serie de medidas para que junto a todas aquellas que resulten necesarias el gobierno siga adoptando en apoyo a la estructura del servicio de atención primaria en el contexto

una reorganización dinámica de los centros de atención primaria que facilite que puedan adaptarse en cada momento a las distintas situaciones que se den en función del grado de incidencia de la pandemia yo creo que este es un principio de realidad básico que hay que asumir

estamos hablando de esta situación planteamos el incremento de la plantilla de atención primaria tanto en personal facultativo como en enfermería y por supuesto

de que la presión de la covid diecinueve disminuya y esto es importante porque es otro principio de realidad

incluyendo la recuperación de la presencialidad garantizando siempre la seguridad de profesionales y pacientes lo vuelvo a decir siempre que lo permita la evolución de la covid diecinueve porque el principio que tiene que regir aquí es el de seguridad para pacientes y para el personal

y se recoge como compromiso continuar con el proceso de reforzar los servicios de enfermería de atención primaria

previamente contratado y se recoge como compromiso seguir reforzando la red de vigilancia con más efectivos y más equipos de rastreo se recoge como compromiso

la reducción de las listas de espera y demoras provocadas por los efectivos de la pandemia yo creo que son compromisos concretos que vienen además a dar una respuesta

en este debate y en segundo lugar el reforzamiento con carácter general del que hablaba que también se recoge en el segundo punto de nuestra enmienda es decir

con independencia ya no como respuesta a las urgencias que nos plantea la covid diecinueve creemos que tenemos que reforzar la atención primaria ampliando y homogeneizando la cartera de pruebas diagnósticas liderando una integración progresiva de la fisioterapia en atención primaria

y actualización de los sistemas tecnológicos impulsar la figura del farmacéutico de atención primaria impulsar la investigación en la atención primaria

sociosanitario pocas veces me verán en esta

leyendo una enmienda muy pocas veces pero creo que es muy importante en este punto

hay compromisos concretos de reforzamiento de la atención primaria para dar solución a cada uno de los puntos que hoy se han planteado por diversos grupos

va en ese sentido con compromisos concretos y eso me parece bastante importante ha habido una enmienda transaccional que se nos acaba

se desarrolla el debate ha habido un intento de los grupos partido socialista y partido nacionalista vasco de llegar a un acuerdo

no ha sido posible y me parece una lástima porque creo que se ha hecho un esfuerzo sincero por llegar a

covid hemeretziari erantzutera bideratuta dago baina jada covid hemeretziarekin ere ezin du terminado de leer este comienzo pensé

solo podía ser alguien absolutamente encerrado en su mundo particular sin una visión ensanchada del mundo que realmente le rodea o bien

para confundir a quien está dispuesto a dejarse ser confundido y esa manipulación solo tenía

de hacer daño como si el que estuviera enfrente no fuera un adversario sino un enemigo he de reconocerle un valor señora ubera la persistencia la insistencia en sus argumentos pero también le voy a decir no por ello tiene más razón

de que en la conversación como en la guerra basta resistir un cuarto de hora más que el adversario

por medio del aburrimiento si es así en mi caso no lo va a lograr mi capacidad de soportar estoico

y porque además tengo muchos muchos años de aguantar de todo y me siento curtido ya a esta edad muy curtido y tras este breve análisis sobre las posturas que cada uno tenemos al comienzo de esta legislatura

para empezar reiteraré también las palabras de la sailburu que comenzó recordándole que la palabra colapso

o ruina de un sistema de una institución o de una estructura y que la actual situación de la atención primaria está muy pero que muy lejos de ese colapso repito no sé por qué se empeña en hablar siempre de desastre de ruina de destrozos cuando usted sabe que no es verdad

para denostar el funcionamiento de todas las instituciones públicas usted sabrá pero si cree que es para sacar réditos políticos no creo que esta es la mejor manera

y sé que las gentes de osakidetza están haciendo las cosas muy bien

los problemas que les ha tocado gestionar al tiempo de querer mantener todos los servicios a la ciudadanía pareciendo reducirse a veces sus palabras deducirse de sus palabras que lo hacen mal a posta porque peor no se puede hacer pues bien cuando usted habla de que osakidetza recupere todas sus ordinarias labores

las labores de testeo y vigilancia epidemiológica está pidiendo que se pongan a trabajar en la materia personal sin perfil sanitario

para eso se están forman do perfiles ya de enfermería auxiliares administrativos fisioterapeutas y trabajadores sociales y son ya más

además la atención primaria no ha dejado de atender a todos los ciudadanos que han acudido a ella lo habrá hecho presencial o telefónicamente pero han sido atendidos y la no presencialidad se ha debido básicamente a que había centros de salud con problemas de espacio físico para gestionar las espera

ya le he dicho que se ha contratado a más de cuatrocientos personas para esa labor por eso nosotros pedimos en nuestra enmienda

porque es la pandemia la que está marcando el uso de la salud pública

daude aurrez aurrekoa ez den laguntza ematen ari direnak hori egiten ari da cuando habla de diferenciar la atención primaria en cada osi

los circuitos están establecidos y diferenciados en los centros que por su estructura física no es posible realizar este circuito se sectoriza en tramo horario primero patología no sospechosa covid y después patología sospechosa luego se está haciendo respecto a atención en patologías leves que también lo solicitan

las y los profesionales de enfermería ya vienen desarrollando desde antes de la covid la gestión de la demanda para una determinada patología aguda

luego también se está haciendo en cuanto a la situación precaria seguro que usted ya lo sabe pero le recuerdo que existe un contrato estable y flexible

también se está haciendo osasun zentroen segurtasunari dagokionez

hau ezarrita dago egiten ari da por cierto muchas de estas cuestiones que le he dicho que se están haciendo ya se le contestaron por escrito desde el departamento de salud es decir la persistencia está ahí puede que todo sea mejorable que lo es

óptimamente si atendemos a su moción la sensación sería que todo está por hacer que todo está manga por hombro que osakidetza más que una organización compleja y muy seria

un avance partiendo de una situación ya muy avanzada no partiendo como parece deducirse de su propuesta de la nada de la indigencia organizativa usted que habla siempre en nombre de la ciudadanía aunque no me haya pedido a mí la opinión que soy también un ciudadano

ya se lo dije la pasada semana amplíe el círculo de sus asesores

son ustedes los que realmente trasladan a la ciudadanía la sensación de un servicio público que parecen una cuadrilla de colegas sin ningún interés por la ciudadanía y eso además de falso

hace menos de un mes cuando según usted estaba ya todo colapsado un estudio de la percepción de la ciudadanía vasca sobre diversos aspectos del covid

señalaron que la respuesta del sistema sanitario de euskadi era mejor que en el resto de comunidades de esto se podría deducir que usted señora ubera

con el uno por ciento que dijo que peor también es probable que diga o piense que ese estudio se hizo como me lo señaló su compañero de escaño públicamente señor casanova

si esto es así pues mire terminamos el debate y se acabó porque insisto

y yo en este segundo término en el del adversario estoy dispuesto a debatir lo que sea

que el sesenta y nueve por ciento de los ciudadanos vascos piensa que el gobierno vasco está teniendo una atención

sacó del siete coma tres notable si usted se queda solo con el seis por ciento que piensa que es mala me parece estupendo

gracias señora presidenta buenos días a todos estamos inmersos en una profunda crisis sanitaria y como

tanto en lo que se refiere a atención primaria como a atención hospitalaria e investigación es más

seguimos en esta situación hablando de la necesidad de reforzar nuestro sistema de atención primaria seguimos sin saber por qué no se ha abordado con seriedad hasta la fecha a estas alturas deberíamos saber ya qué hacer y qué no hacer deberíamos haber reforzado los equipos de profesionales

sobre los nuevos roles de nuestras enfermeras sobre un mejor modelo de atención a la cronicidad

potencial de la enfermería comunitaria estoy de acuerdo en muchos de los puntos que se han traído a esta cámara hoy por parte tanto del grupo proponente como enmendantes

retomen su ocupación sanitaria y deleguen estas nuevas funciones en personal administrativo previamente

también creemos que osakidetza debería de enseñar una estrategia coordinada de rastreo seguimiento y vigilancia epidemiológica de la covid hemeretzi aunque parece obvio que vamos tarde muy muy tarde

no he visto mención alguna a todos esos profesionales sanitarios tanto de la atención primaria como hospitalaria que se fueron de euskadi por la imposición de un determinado nivel de conocimiento de euskera

también podíamos hablar de rebajar esas condiciones para que en euskadi pudiéramos contar con profesionales que llegados de otros puntos de españa

algo impensable en el contexto actual aunque sea más que necesario

también para debatir sobre la enfermería que necesitamos y el mejor uso de los escasos recursos de los que disponemos especialmente escasos en un momento de crisis como el actual

del sector en euskadi entre ellos las exigencias excesivas que repercuten de forma negativa y la disposición de profesionales que hoy tanto necesitamos señor tellería atención telefónica en muchos casos no tiene sentido no puede ser valorada una afección sintomática a través de una línea de teléfono
creo que en la carrera de medicina no hay formación para ello eskerrik asko eskerrik asko martínez andrea

todo está bien todo está perfecto todo se está haciendo

entonces no entiendo el porqué de las movilizaciones el porqué de las huelgas no entiendo todo lo que están los profesionales de la salud no sé no sé igual quizás si nos escuchásemos más entre nosotros y colaborásemos más

si trabajásemos más conjuntamente quizás entre la

y la que hacen ustedes igual puede haber un intermedio pero sobre todo les tendríamos que escuchar más y trabajar más con los que están en la primera línea y un poco de autocrítica no solo a ustedes todos pero ustedes también

porque la autocrítica yo creo que es un buen compañero de viaje y nos ayudaría a avanzar y a ser mejores begira

un diagnóstico sobre la situación en estos momentos de la sanidad pública vasca y de la atención primaria

y yo encuentro que en ese diagnóstico hay una

la enmienda que han presentado partido nacionalista vasco partido socialista de euskadi con luego

tellería porque creo que en la enmienda que ustedes presentan de alguna manera se reconocen algunos de los problemas que estamos teniendo algunos de los problemas que tiene en estos momentos sobre todo la atención primaria

de pintar cuando otros grupos parlamentarios plantean las situaciones y sobre todo cuando lo plantean

de plantear también esa especie de acusaciones de que lo que se intenta es utilizar políticamente

como que otros grupos y los sindicatos están intentando

desde luego mi grupo creo que y así lo creo creo que en mi intervención de hoy

a intentar describir un infierno en la actual sanidad pública para alentar no sé a las masas a no sé qué especie de acción u opinión contraria del gobierno

actual y los problemas son reales y los problemas que está teniendo la ciudadanía

de acceder al sistema y en especial en atención primaria están ahí son serios los hemos visto

en los centros de salud etcétera y creo que cuando los profesionales de la sanidad pública

una serie de situaciones pues creo que les debemos

y yo entiendo que ustedes puedan no compartir su posición pero creo que sí que tenemos que tenerles

porque aunque también los sindicatos tengan sus estrategias incluso políticas joe los sindicatos representan a las y los trabajadores en la sanidad pública nosotros la semana que viene traemos una

o una moción perdón fruto de una interpelación que hicimos a la consejera precisamente centrada en ver cómo hay que responder o como creemos que el gobierno tiene que responder

a esas demandas y lo que le pedimos al gobierno es que más allá

discursos que le puedan parecer más o menos duros sobre el diagnóstico

toda la credibilidad y la seriedad del mundo a los planteamientos que están haciendo desde los sindicatos porque sabemos que no solo están buscando la mejora de sus condiciones de trabajo

y la mejora en concreto de la atención primaria y por tanto la semana que viene volveremos con este tema y volveremos a discutir nosotros no hemos venido a describir

el sistema tiene ahora problemas reales y sabemos que en este momento es muy difícil que es causa de la pandemia y por eso lo que nosotros

es que el sistema esté preparado para dar la atención ordinaria también con la pandemia porque ahora estamos en el segundo pico pero es perfectamente verosímil

esperan que llegue en los próximos días y descienda posteriormente pues nada nos dice que no volvamos a tener un tercer pico

para que nuestro sistema en ese escenario pueda dar la mejor atención sanitaria a la ciudadanía en el caso de las patologías voy a decir ordinarias las patologías de no covid porque en este momento pues no se está haciendo en la primera ola era absolutamente comprensible

menos comprensible y en un futuro escenario pues será aún menos comprensible eso es lo que creemos que hay que hacer besterik es eskerrik asko eskerrik asko hernández jauna

yo llevo años en este parlamento y escuchando mucho a colectivos asociaciones a profesionales

de medidas en este momento medidas que puedan ser urgentes para paliar la situación en la que puede encontrarse la atención primaria hombre yo no sé señor tellería si es catastrófica como

eh bildu en su exposición lo que está claro es que la situación no es buena eso hay que reconocerlo pero claro ya usted la ha calificado casi bueno creo que ha utilizado la palabra de óptima

creo que también los grupos que apoyan al gobierno no sé si también por la situación de mayoría

no necesitan ningún otro grupo de la cámara pues también roza en demasiadas ocasiones la autocomplacencia le digo también al señor rico y al señor

da la sensación de que nuestra sanidad esta perfecta que estamos muy bien que no hay ningún problema no yo creo que el escenario no es para nada ese y que yo creo

de dónde están las deficiencias para poder abordarlas y la realidad es que la gestión del covid diecinueve ha aflorado muchas cuestiones que estaban ahí problemas incluso estructurales que han aflorado y los ha permitido ver vamos a sacar también lecciones de todo esto nos ha permitido

problemas y cuestiones que no funcionaban bien en nuestra sanidad rectifico señora ubera sí que es cierto que no es que no me ha dado tiempo a leer la enmienda de transacción en su integridad que han incluido el párrafo de mejorar la atención domiciliaria y telefónica y equipos del consejo sanitario y servicio del ciento doce

me dice la consejera que no yo tengo apuntado que usted señaló seiscientos en dos ocasiones el personal dedicado a labores de rastreo en cuanto a las consultas otro tema que también nos decía el señor tellería que muchas consultas no se pueden realizar de forma presencial porque hay limitación de espacio en los centros de salud bueno limitación de espacio en los centros de salud

que ese problema estaba ahí no ha quedado evidenciado y puesto de manifiesto en esta crisis quiero decir que antes ya había problemas usted que es de vitoria conoce el pac

se han realizado inversiones y muchos centros de salud

se han construido nuevos hay nuevos centros de salud precisamente también por el impulso que ya se les dio aunque el tanto se lo quiso apuntar también el señor darpón por el impulso que se les diera a algunos de ellos en la legislatura en la que pillamos al partido

y de salburua concretamente en vitoria como también otros en otros territorios el problema de las consultas presenciales es que llegan a lo que llegan el otro día me decía una paciente

que tenía una revisión de cardiología y que vamos que se la querían hacer de forma telefónica eso es impensable quiero decir que hay que ver las atenciones presenciales para qué tienen que estar

se tienen que seguir realizando de forma presencial y por otra parte bueno claro telefónica pero si llamas para intentar concertar una cita telefónica y no hay forma de que te cojan el teléfono pues también habrá que reforzar las consultas telefónicas

efectivamente ese déficit está ahí estaba ahí y ahora se ha agudizado pero tampoco podemos hacernos trampas en el solitario es decir si ponemos también barreras

para que vengan profesionales como puede ser la barrera lingüística pues obviamente los profesionales se los van a llevar a otras comunidades autónomas porque si aquí

sanidad pública pues decidirán irse a otras comunidades autónomas en definitiva

este virus pero bueno ahí está también la amenaza de que tenemos que estar absolutamente preparados y con un sistema de salud fortalecido

a futuras pandemias que pueden venir por lo tanto creo que también es importante que aprendamos de los errores y que este gobierno también en esta materia concreta pero en conjunto de la sanidad

y mejore aquellos aspectos que actualmente en la atención que está dando se ha comprobado que son deficientes besterik gabe eskerrik asko eskerrik asko garrido andrea

gracias presidenta a mí me llama la atención y de verdad que me llama la atención no solamente en estos muros

verlo en diferentes instituciones incluso ajenas al ámbito de euskadi el intentar parcelar algo que ha afectado a todo el mundo si algo nos ha enseñado esta pandemia es que no entiende de fronteras y que esta pandemia está afectando absolutamente a todo el mundo

se hacen parcelaciones de no es que miren lo que está pasando aquí

vamos a ampliar un poco el horizonte que estamos viendo y vamos a ver qué es lo que está sucediendo en todo el mundo

y veremos que no difiere sustancialmente lo que está pasando en unos sitios y lo que está pasando en otros

no me ha gustado señora ubera cuando ha salido aquí todo está bien todo está perfecto no

nada está bien y nada está perfecto nada está bien y nada está perfecto porque la pandemia ha puesto patas arriba absolutamente todo en todas partes

decisiones que además no se toman permítame el ejemplo aquí de forma diferente a como se toman

porque además existen organismos de coordinación que nos llevan a tomar decisiones muy parejas y yo señora ubera se lo digo

la señora garrido autocomplacencia yo creo que autoexigencia

creo que se ha leído bien la enmienda porque antes ha salido en el primer turno y ha llegado a decir que incluso coincidía con esa segunda parte de ir más allá de la propia gestión de la urgencia pero en este relato de su segundo turno se

diciendo es que evidentemente de cómo se ha hecho frente a esa primera oleada hemos aprendido

hemos sacado conclusiones y que creemos que tienen que ser incrementadas claro que sí y por supuesto señora ubera que se tiene que ir acompañada de actuaciones tiene que ir acompañada de compromisos presupuestarios en el pasado pleno hablábamos de esto incluso

con el partido popular que recogía que tenía que haber compromisos presupuestarios para el desarrollo y la articulación de toda la estrategia sanitaria evidentemente con el partido popular y con ciudadanos que a veces

pero esa es la realidad la realidad es que las cosas las cosas

en ningún ámbito y estamos haciendo frente a una situación que es absolutamente difícil

por delante de la pandemia siempre vamos detrás del virus hombre

le plantea que es hasta lógico tomar decisiones en base a analizar las decisiones precedentes y los resultados que estas han dado

uno va al médico cuando está enfermo no antes de estar enfermo claro evidentemente es que yo creo que eso es algo bastante

conseguido una transaccional porque de hecho después de haberla leído en muchos puntos yo creo que la oferta que le habíamos hecho de transaccional el partido nacionalista vasco y partido socialista la que habíamos retomado usted efectivamente

le lanzamos otra tenía muchos puntos de acuerdo

no sé si se han puesto para que precisamente no las podamos asumir

yo creo que poco a poco tenemos que tratar

en trasladar lo que yo creo que de verdad quiere la ciudadanía y aquí se nos dice qué quiere la ciudadanía bueno yo también soy parte de la ciudadanía coincido con el señor

lo que me dice es que nos pongamos de acuerdo eso es lo que me dice que no podemos salir aquí a echarnos los trastos a la cabeza que nos tenemos que poner de acuerdo y voy a acabar con esto hemos visto

y en las propuestas de soluciones tenemos muchos puntos de acuerdo

mahaiburu andrea miren yo vengo tiempo dándole vueltas por qué mi grupo parlamentario me sugirió ser portavoz de salud porque era un tema que yo no controlaba y he llegado a una conclusión

el mayor usuario desde luego del grupo parlamentario y casi seguro de todo este parlamento de los servicios públicos de salud vascos y

y en pandemia incluido no he tenido ni un solo problema

pues ha habido varios meses que no era nada de parlamentario y me seguían atendiendo no era ni parlamentario ni nada era un ciudadano normal y corriente

de un grupo parlamentario y yo soy el ciudadano al que pregunta le digo fenómeno

no he dicho en ningún momento que todo está perfecto en ningún momento si no no hubiéramos metido una enmienda con un montón de mejoras que quiere decir que hay que seguir avanzando

a decir lo que se dice ni estoy dispuesto y yo voy a respetar cómo no voy a respetar a los sindicatos

a decir que esto es un infierno porque realmente si uno escucha lo que dijeron es un infierno y que el lehendakari y todos sus consejeros prácticamente desde febrero se reunían cada mañana a las siete para ver no solo cómo hacerlo mal sino cómo jorobarnos a los ciudadanos prácticamente es lo que dijeron

por ahí no voy a pasar porque creo que hay que ser medianamente objetivo y sincero y aquí no se es sincero se manipulan las cosas y por ahí no voy a pasar es lo mismo que una transacción yo cuando he visto la transacción que han presentado ustedes

otra cosa es que transaccionar no es que acepten lo mío

es buscar un punto intermedio de acuerdo y yo tengo la mejor disposición perdone señora ubera usted colocó todo lo suyo

y por ahí no voy a pasar por ahí no voy a pasar es ceder quite usted cosas suyas

y podemos llegar a un acuerdo mi disposición es grande llegamos a cruzarnos vale usted antes había llegado elkarrekin podemos y después de haber llegado con ellos ya me avisó que no había nada que hacer conmigo

vale pero es lo que hay esto es lo que hay en cualquier caso les voy a decir

seiscientos personas trabajando en rastreo y yo he hablado de cuatrocientos contratados hay seiscientos trabajando o setecientos ahora me dice la sailburu setecientos

al treinta por ciento de los ciudadanos cada día entre diez y quince mil personas se hacen pcr o antígenos

vacunadas de gripe la pasada semana se atendieron

eso es un signo de colapso eso es colapso

si funciona es porque los trabajadores dan el callo si no funciona es porque la organización es nefasta

evidentemente no les voy a quitar a los trabajadores todo el mérito que tienen pero la organización quienes mandan en la organización algo tendrá que ver es decir en ese sentido

señora martínez supongo que habrá muchas patologías que no se pueden pero es un buen triaje para ir seleccionando y filtrando

miren señora ubera

al día siguiente que lo hacemos todo mal un día

desarrollar cuanto antes a tope el deporte escolar al día siguiente que hay que cerrarlo todo sí sí sí le felicitan a trump

sean consecuentes sean consecuentes hasta el dos mil diecinueve

no se ni en madrid no se podía ir ahora ustedes pactan y son los mejores

permanente es muy difícil negociar con ustedes sean más consecuentes trabajen y

lo único que pedimos es fidelización y negociar con madrid
ya que ahora ustedes van a pactar el presupuesto pacten ustedes los mir que tienen que venir a euskadi muchas gracias eskerrik asko tellería jauna

en tres ideas la primera de ellas ya la he repetido más de una ocasión en mis intervenciones en el pleno y es que desde nuestro grupo consideramos que

así como la previsión de gasto para el dos mil veintiuno es

y empezaremos por lo más reciente que es básicamente la aprobación de la modificación de la ley de presupuestos para el año en curso que ya se tramitó hace un par de semanas pero que da cuenta

no contemplaban la situación actual de pandemia no pueden ser abordados de la misma manera que cuando se aprobaron es decir con una previsión de gasto prácticamente similar

teniendo en cuenta la necesidad de gasto público no puede ser que la pretensión de endeudamiento del gobierno vasco básicamente básicamente se base

en remanente de tesorería y cincuenta millónes en reasignación de partidas que es básicamente lo que el consejero azpiazu más allá de la cifra de endeudamiento

no nos parece que esto se pueda definir como unos presupuestos cuenta de la realidad de prácticamente economía de guerra que estamos viviendo pone en entredicho frases del tipo nos endeudaremos

que desde luego no es todo lo que hace falta en estos momentos la mayoría de los grupos parlamentarios de la oposición es verdad que con diferentes argumentos

toma en consideración pero yo creo que sí que subyacía una idea general por parte de todos los grupos o en las intervenciones de prácticamente todos los grupos de la oposición y era que la sensación latente tenía mucha correlación con que la política de presupuestos del pnv y de quien le acompaña que es el partido socialista no ha cambiado prácticamente nada es decir

asumiendo que la entrada en déficit es decir incurrir en déficit simplemente tiene que estar limitada a un ajuste presupuestario es decir que no hogeigarrena zintaren amaiera hogeita batgarrena zintaren hasiera entrada en déficit es decir incurrir en déficit simplemente tiene que estar limitada a un ajuste presupuestario es decir que no podemos incurrir más allá

necesario desequilibrando las cuentas es corroborar que pase lo que pase no se va a hacer uso de las facultades que nos da el autogobierno

y ciudadanos una pandemia que ha puesto la economía mundial en hibernación

derrumbadas las cadenas de valor global que se detienen el comercio internacional que se contrae y en euskadi según las propias estimaciones del gobierno vasco con contracciones del pib este año ligeramente por encima del diez por ciento cifras para las que no existen precedentes en tiempos de paz con el consumo en los hogares contrayéndose

es decir una quinta parte menos que en el mismo periodo de dos mil diecinueve ante esta situación cuál es la receta que pone sobre la mesa el gobierno vasco un enorme paquete de estímulos miles de contrataciones públicas en osakidetza educación pública o los servicios sociales de base un plan de reconversión industrial con estímulos para dar el salto hacia otra matriz productiva no básicamente

manida que se pone encima de la mesa no habrá recortes es decir nos encontramos ante la peor crisis del último siglo y básicamente lo que el gobierno vasco pretende hacer que nos contentemos con no insistir en las recetas que han arrasado nuestra economía la última década se han incrementado las desigualdades se ha debilitado los servicios públicos

se han externalizado servicios y a la vez se han gastado miles de millónes

que no tienen un pase desde el punto de vista medioambiental social ni económico pura doctrina neoliberal recortar sí pero para las mayorías

siempre es navidad estos datos consideramos que son suficientes como para tirar por la ventana el modelo que lo confía todo al sector privado

el consejero el modelo que prefiere que el estado

corporaciones el consejero azpiazu nos asegura

será expansivo que se abandona la austeridad que apostarán por no dejar a nadie atrás pero ya digo y teniendo en cuenta el presupuesto de dos mil veinte básicamente

más allá de esa cantidad nada obras son amores y no razones cuando observamos las tasas de referencia que se han autoimpuesto

nos convencemos de que en el fondo el gobierno vasco sigue más preocupado por cuadrar como decía antes los presupuestos

y liderar desde lo público el estado español ha asumido un doce por ciento de déficit que le permitirá gastar

este año mientras que las restantes comunidades autónomas de régimen común tiene un objetivo de déficit del dos coma dos por ciento sin embargo euskadi que tiene capacidad normativa y recaudatoria en el ámbito fiscal podría no solo asumir un déficit mayor esto son tasas de referencia de lo que estamos hablando sino que además una mayor capacidad de gasto en el futuro independientemente del nivel de déficit aumentando el ingreso fiscal cuestión que

veces mencionamos en este pleno y nunca se quiere abordar no hacerlo pero mantener un discurso de presupuestos expansivos y deuda sin fin es cinismo puro y duro no se corresponde con la realidad nosotras y nosotros creemos que las herramientas del autogobierno deben ponerse al servicio de las mayorías

multimillónarios no ha crecido el patrimonio de las grandes fortunas en la última década precisamente cuando el grueso de la población vía sus ingresos

que se suma en una situación de precariedad que sus hijos tienen que abandonar este país para buscar oportunidades fuera el gobierno vasco ha favorecido en repetidas ocasiones fiscalmente

ahorro con la excusa de que el ahorro se canaliza vía inversión y esto es falso la política fiscal tiene efectos multiplicadores en potenciar el desarrollo económico por medio de los salarios

y prestaciones que sostienen el consumo por ejemplo gastar en crear empleo público en sanidad o en educación es sinónimo de ampliar la base salarial de la economía vasca

que con una reforma fiscal como la que se está planteando se haría detrayendo recursos de quienes atesoran acumulan o invierten en mercados financieros o inmobiliarios

impuestos para poderlos orientar a un gasto que precisamente permite generar crecimiento en realidad no está defendiendo los intereses de la mayoría social vasca sino los intereses de una minoría acomodada y pudiente

empresarial tras el que esconden los intereses concretos de las élites económicas y financieras

los costes y precios no son los únicos factores de competitividad ni muchas veces los principales

fiscales de las empresas tampoco suponen la parte principal de sus costes y tampoco determinan su competitividad qué ha pasado con el impuesto de sociedades desde que ustedes lo rebajaron hasta el ridículo por cierto en compañía con el partido popular toda la capacidad

para los ricos para las multinacionales para los fondos financieros internacionales y para rebajar como decía el impuesto de sucesiones en repetidas ocasiones

no ha contribuido a la competitividad no ha cumplido ese mantra que tanto se verbaliza esta espiral de rebajas ha deteriorado los servicios públicos fundamentalmente

los servicios sociales a todos los niveles administrativos la educación pública pero sobre todo ha consolidado una euskadi de dos velocidades los grandes patrimonios y fortunas que se han incrementado exponencialmente

reducida de forma abrupta mientras la recaudación del impuesto de sociedades en un buen año como fue dos mil diecinueve cayó un diecisiete por ciento fruto de las reformas adoptadas el impuesto de patrimonio a su vez también lo declaran cada vez menos personas diez mil contribuyentes vascos y vascas y recauda a penas ciento sesenta y siete mientras esto ocurre los rendimientos del trabajo siguen sosteniendo la capacidad fiscal del gobierno vasco de las diputaciones

tienen una presión fiscal menor que euskadi y no son precisamente ni los más competitivos ni los que mayor crecimiento ni los que crean mayor mejor empleo de calidad son exactamente grecia república checa letonia y eslovaquia este es el modelo al que aspiramos

diferentes consejeros y consejeras en relación con asemejarnos con las locomotoras de europa y esta razón esta situación

implica que tenemos un estado social insuficiente y mal dimensionado para el nivel de desarrollo de euskadi pero además y como ya decía antes se recauda mal

permanentemente la carga fiscal la presión fiscal sobre los rendimientos del trabajo en las aportaciones en impuestos directos el treinta y cinco por ciento del total de la recaudación

que lo hacen las rentas del capital y voy a terminar con la tercera idea que se refiere a la capacidad que tiene el gobierno vasco normativamente hablando para tratar esta cuestión y me refiero a la política fiscal desde elkarrekin podemos hemos presentado una reforma fiscal armonizada en los tres territorios históricos

la capacidad que tiene el gobierno vasco de afrontar esta cuestión la capacidad que tiene el gobierno vasco es básicamente la de la armonización fiscal y la de los recargos la situación a la que nos enfrentamos tiene tanto de desastre natural como las riadas de mil novecientos ochenta y tres

las capacidades de esta cámara en juego para hacer frente a este cataclismo

económico por eso desde elkarrekin podemos izquierda unida vamos a seguir instando a esta cámara a trabajar en esa dirección no nos podemos permitir seguir instalados en la misma lógica no podemos permitir que los excesos

lo vuelvan a pagar los y las de siempre frente a palabras vacías creemos que por responsabilidad

hay que poner en marcha todas las capacidades de autogobierno de las que dispone el gobierno vasco la obligación de esta cámara es buscar soluciones materiales es hoy más necesario que nunca poner la facultad del autogobierno al servicio de la gente

confiere al parlamento vasco la competencia de establecer recargos entre otros en el impuesto

por citar algunos ejemplos de hecho el artículo treinta y cinco de esta ley señala que el parlamento vasco podrá establecer recargos en estos impuestos a través de leyes a tal efecto

instaremos en las próximas semanas mediante una proposición de ley de recargos con urgencia a que el gobierno vasco

y ponga en marcha la aplicación de recargos para tener ingresos un esfuerzo adicional en relación con el gasto

de pandemia y también de falta de recursos insisto

adecuado desplegar las facultades fiscales que le son reconocidas al parlamento con el objetivo de dotar presupuestar y gastar

que estamos viviendo no nos podemos limitar a compensar las bajadas de recaudación permanentemente tenemos que abordar el presupuesto una manera expansiva y para ello tenemos utilizar todas las herramientas de las que disponemos

en el plano de las diputaciones o de las juntas generales así como utilizar los recursos de los que dispone esta cámara para poder abordar la profunda crisis económica

comienzo de la legislatura estamos con la batalla de eslóganes la batalla de la demagogia fin de la austeridad dicen unos se acabó el austericidio dicen otros

científico técnicos de nuestro tiempo tratan del mismo modo que en la edad media confinamiento

pero con este nivel no hay deuda que nos salve desde vox estamos de acuerdo en que dadas las circunstancias de la crisis si los recursos no llegan para salvar empresas

y por supuesto salvar familias entonces hay que acudir a la deuda tenemos que resistir la naturaleza de esta crisis con limitaciones tan graves como las anunciadas la pasada semana hace que lo fundamental sea resistir no sabemos hasta cuándo pero la administración tiene que proteger nuestro sistema productivo y nadie duda de esto ahora bien

minutos y minutos de discurso de palabras vacías para decir a la austeridad y con esto está todo dicho para que digan el que quiere entender que entienda es una desfachatez infinita creer que con ese eslogan ya está todo dicho la deuda no es ningún regalo y no lo es porque hay que devolverla nuestros hijos la devolverán y la economía se basa en la confianza

siglos en construir y solo unos minutos en destruir hay que mejorar los servicios por la vía del endeudamiento

no es necesario realizar recortes como si recortar fuese malo por naturaleza pero es que uno no puede endeudarse

tenemos que conseguir la sostenibilidad y por la vía de la reforma de la reforma fiscal que proponen esto es subir aún más los impuestos

y es más que probable que con esa idea de subir y subir los impuestos lejos de conseguir recaudar más consigamos precisamente todo lo contrario claro que hay que recortar

recortar en gasto político e ideológico esto no es nada nuevo en todos los aspectos de la vida así se ha hecho cuando nos va mal hay que recortar en lo superfluo así lo hacían nuestros padres así lo hacen las empresas pero en política según dicen parece que no es así

solicita una bajada radical de los impuestos indirectos

con ello qué queremos conseguir una reactivación total del consumo si en dos mil veinte fue el año de la resistencia el dos mil veintiuno tiene que ser si las circunstancias lo permiten el año de la reactivación y por ello desde vox creemos necesario realizar una bajada de impuestos

voy concluyendo lo cierto es que hablan de endeudamiento

que tenemos por primera vez en tiempo un gobierno vasco con dos vicelehendakaris y que los fondos europeos se reparten no se sabe cómo hay grandes empresas alavesas que nos llaman preguntando cómo acceder a ellos

los comerciantes tres cuartos de lo mismo a este paso no va a hacer falta endeudarse para resistir tendremos que llamarlos fondos de reconstrucción porque no quedará nada

azken batean krisi honen ondorioak ordaindu beharko dituztenak se nos dice que no toca una reforma fiscal el problema es que no toca nunca

cómo no va a tocar si precisamente nos encontramos en una situación en una coyuntura en la que como digo se han reducido drásticamente los ingresos cómo no va a tocar

si la fiscalidad actual sigue recayendo fundamentalmente en las rentas de trabajo cómo no va a tocar si como decía el compañero de podemos también en esta situación de crisis económica y social sin parangón hay empresas

o como el bbva que incluso han mejorado resultados cómo no va a tocar gravar a esas empresas los beneficios de esas empresas cómo no va a tocar gravar a las rentas más altas por supuesto que toca hasta el fmi está demandando una fiscalidad

la otra vez que el acuerdo alcanzado en el seno de la comisión mixta del concierto económico y que fijó el déficit en ese dos coma seis

es un ejemplo de bilateralidad y autogobierno y nosotras décimos que ciertamente es un ejemplo lo es de la situación de subordinación y sometimiento de este pueblo

los contenidos e incluso esa cifra final del dos coma seis ha sido madrid

y nosotras ese acuerdo da la medida real de nuestro autogobierno madrid decide y por si eso fuera poco nosotras parecemos obligadas a celebrar

ruinoso y en definitiva una birria en comparación sí con el que alcanzó euskal herria bildu con los gobiernos que sostienen con los partidos que sostienen el gobierno español y que daba la posibilidad como he dicho

presidenta diría miembros del gobierno pero no veo ninguno señorías portavoces bien la verdad es que esto de las mociones

uno sabe cómo empiezan pero no cómo acaban no porque aquí el señor soto presentó una moción con la que yo estoy totalmente en desacuerdo mi grupo también

al final han llegado a un acuerdo con bildu y bueno y ustedes han intentado defender su propuesta bildu

la utiliza para incrementar esa tensión creciente

por el partido nacionalista vasco y mire yo voy a hacer una cosa voy a ser honesto con la propuesta que usted hizo

a lo que inicialmente se propuso pues mire no me gusta vamos a ver comparto el diagnóstico que usted hace la situación es mala y puede ser peor es cierto que

desde los órganos públicos pero hay que prepararse siempre hay que estar preparados para lo peor comparto el diagnóstico

pero en absoluto comparto sus propuestas y mire le voy a decir porqué

que básicamente desaparece se lo han medio redactado en el punto uno de la transacción de la transada pues habla de una ley de presupuestos de carácter expansivo

no no es momento del carácter expansivo imagino que implica

hacer políticas económicas contracíclicas hombre políticas económicas contracíclicas sí lo que pasa que creo que para usted y para mí políticas contracíclicas son distintas

para mí una política contracíclica sería bajar los impuestos para permitir que se recupere la actividad económica y que de ahí a medio y largo plazo se recupere también la capacidad recaudatoria y con eso efectivamente poder financiar el sector público que vamos eso es el abc creo yo del sistema ordoliberal que no neoliberal

lo usan a veces imagino que intento que como un insulto pero hasta ahora nunca han explicado lo que es esto de ser neoliberal díganlo porque

que se basa o que esencialmente parece que recoge un plan fiscal en profundidad y en el que además hace referencia usted a la equiparación fiscal de euskadi con el resto de europa mire me voy a detener en este punto porque es un

es un mantra esto de la equiparación de la presión fiscal que además está utilizando

tienen un pacto de gobierno a nivel nacional la señora montero también

que básicamente quiere decir oye no me salen las cuentas sube los impuestos para compensar esto es un argumento habitual pero es un argumento falso un argumento falso por no decir

mire se suele decir que la diferencia entre la presión fiscal de media europea países de la eurozona porque hay que

una pequeña variación pero en fin también ese es parecido no se puede comparar la situación de la presión fiscal en el caso europeo

la de euskadi por varias razones primero porque el nivel de paro es mucho más alto en españa el paro estructural

mucho más alto en españa que en el resto de europa esto hace como usted bien sabe cuando hay más paro evidentemente tiene que haber un desvío de recursos públicos para intentar paliar en la medida de lo posible la situación de las personas en desempleo y al final

con lo cual evidentemente una vez más se recauda menos en segundo lugar el pib per cápita es quince puntos inferior a la media de la eurozona es que nuestro pib per cápita la renta per cápita vamos por simplificar

con lo cual tampoco partimos de los mismos parámetros de comparación en tercer lugar y esto le va a encantar es que la deuda externa española

bastante más baja ciertamente pero también nos afecta la deuda del común del estado pues es que la deuda externa

claro tener una deuda muy alta qué implica hombre si te mantienen los tipos de interés a cero

gloria pero hombre es que esta situación no sabemos cuánto tiempo y aparte es que escapa del control y de la capacidad de control de las autoridades nacionales yo entiendo que están acostumbrados

de lo que fue la política económica franquista les voy a citar

los postulados de su propuesta económica siempre es que son absolutamente idénticos al de la economía franquista que es el proteccionismo muchas veces no bien entendido de forma coyuntural sino unas políticas económicas que van en contra

le mencionaré un poco son políticas que solamente buscan compensar por lo fácil en la época franquista sabe usted que era la devaluación de la peseta

y al final nunca se acaba de recuperar el empleo que sigue siendo que sigue siendo muy alto por cierto otra

la fijación de los precios del alquiler mire usted lo que costó recuperar un poco el mercado de alquiler pero bueno hay también

de economía sumergida como usted bien sabe y predominio de pequeñas empresas

el problema del músculo de las empresas les hace siempre como usted bien sabe más débiles y más permeables a las situaciones

de medidas muchas veces en situaciones que nadie podía esperar como la pandemia el caso de la hostelería que encima hemos empezado la casa al revés ha sido como entrar en una cacharrería oiga primero

ausencia total de seguridad jurídica que es absolutamente lo peor que puede pasar en la economía

en otro punto pero me sorprende mucho lo que usted ha hablado del típico mantra este también de los plazos e impuestos que pagan las empresas mire es que hay un tema es cierto que

las cotizaciones sociales que se pagan en españa son proporcionalmente muy superiores con lo cual si uno suma

por trabajador más lo que es el tipo impositivo específico

absolutamente no hace falta ni que se lo diga verdad ya sabe lo que pienso en absoluto no es momento ni ahora

una subida de impuestos es un fracaso es un fracaso de la gestión pública en sentido amplio euskadi es la comunidad autónoma en realidad los tres territorios históricos que la componen que son los que tienen competencias fiscales esencialmente que graba más

en su intervención hay muchos asuntos en los que se puede también recortar es que ya no quiero entrar en otros temas

o que en euskadi tenemos un informe por ahí que se hizo en su momento

sobre solapamientos en la administración pública que es otro problema que hay

ahí se hablaba de la necesidad de simplificar la estructura administrativa y ahí se hablaba de la posibilidad de ahorrar

en solapamientos para invertirlo en políticas sociales por supuesto que sí por tanto

no qué es lo que hay que hacer y ya entro

pues mire coincido con usted en que lo que hay que hacer es presentar un presupuesto con un contenido específico pero para eso es necesario que el consejero

es necesario que se presente un presupuesto pero con medidas específicas que permita el crecimiento otra vez y la recuperación del empleo y no subir impuestos

es muy importante aumentar también la coordinación con los órganos económicos y también con los órganos en materia impositiva tanto en euskadi como en españa porque es muy importante así como la pandemia no puede ser analizada solamente en términos locales como decía antes un compañero de la otra bancada tampoco en asuntos de economía y luego finalmente todo ello desde la sinceridad porque hay que ser sinceros en el diagnóstico y la situación la seguridad jurídica y la transparencia muchas gracias

los socialistas vascos no hemos presentado una enmienda a la iniciativa del elkarrekin podemos e izquierda unida porque nuestra posición respecto a los presupuestos para euskadi

y sobre los mecanismos fiscales que tiene este parlamento pues está claramente expresada desde la novena legislatura en todos los debates que hemos mantenido en esta cámara respecto a los ingresos y a los gastos de los sucesivos presupuestos

que apoyamos la propuesta y la respuesta que el consejero de economía y hacienda nos dio ante la interpelación de elkarrekin podemos izquierda unida cuando en el pleno

de octubre dio el consejero sus explicaciones y no hay más que ir al diario de sesiones de esta cámara yo voy a intentar exponer cuáles son los argumentos que los socialistas vascos damos a los tres planteamientos que ha hecho en su iniciativa original elkarrekin podemos izquierda unida primero respecto a la elaboración de los presupuestos de dos mil veintiuno el pasado veintiuno de octubre el consejero en su comparecencia para explicar las líneas estratégicas de la acción de gobierno

en cuanto a la política económica y presupuestaria de su departamento haciendo referencia al programa de gobierno para el año desde el año dos mil veinte al dos mil veinticuatro que esta política se basa en tres principios garantizar la salud la reactivación económica y del empleo y no dejar a nadie atrás en ninguno de los parámetros que definen a una sociedad cohesionada como la mejor inversión para este país

está el de la gestión de los recursos públicos de forma responsable siguiendo con una política presupuestaria basada

y la sostenibilidad de las finanzas públicas las directrices presupuestarias que van a marcar la elaboración de los presupuestos para dos mil veintiuno se aprobaron el seis de octubre

para los que se descartan la austeridad y los recortes en las políticas públicas unos presupuestos en los que la salud y la educación van a recibir un importante impulso presupuestario

que en el escenario previsto estaremos ante unos presupuestos en los que se va a abordar la reactivación económica se van a revitalizar los sectores más afectados por los cambios de la demanda el impulso a la consolidación fiscal y en los que se van a impulsar programas dedicados a reforzar

el esfuerzo en inversiones va a quedar planteado en estos presupuestos recogiendo además

para dejarlo más claro yo me remito a la comparecencia del consejero el señor azpiazu el pasado veintiuno de octubre cuando entre

como un horizonte del departamento de economía y hacienda elaborar y diseñar el presupuesto del año que viene de manera

sin retrocesos en el gasto y con cierta osadía en el planteamiento general los parámetros o claves de los ingresos serán el endeudamiento hasta el máximo posible y no la austeridad para cubrir los gastos a los que hacer frente sin restricciones

la senda de estabilidad presupuestaria y consolidación fiscal habremos de retomarla y habremos de estar preparados

que el límite de déficit la ruptura de las reglas de estabilidad presupuestaria entendidas de manera racional y la previsión de ingresos aprobada por el consejo vasco de finanzas auguran una posibilidad de presupuesto de carácter como decía moderadamente expansivo

segundo asunto que plantea el señor soto en su iniciativa la reforma fiscal en el ámbito de los ingresos para los presupuestos de dos mil veintiuno hay que tener en cuenta el acuerdo de la comisión mixta del concierto económico

el acuerdo del consejo vasco de finanzas de quince de octubre por qué porque permiten la conjunción de una capacidad de déficit y de endeudamiento relativamente amplia entendida como referencia y así como unos mayores ingresos presupuestarios vía aportaciones de las diputaciones forales que plantean un repunte en los ingresos en dos mil veintiuno respecto al cierre del ejercicio dos mil veinte

de dos reformas fiscales en euskadi la de dos mil trece y la de dos mil dieciocho en el actual acuerdo y programa de gobierno

además de comprometernos a esa gestión rigurosa de los recursos públicos

en el avance hacia una fiscalidad más progresiva y equitativa mantenemos junto con las instituciones forales la voluntad de proceder a esa revisión de la fiscalidad si bien esa revisión debe tener en cuenta la nueva realidad económica surgida tras la crisis de la covid diecinueve

las capacidades y competitividad de las empresas así como las aportaciones extraordinarias que están previstas por el gobierno de españa y en la proporción que nos corresponda de la unión europea la revisión de la fiscalidad requiere primero una evaluación y reflexión compartida con las instituciones competentes porque pretendemos que esa revisión fiscal sea adecuada a la nueva realidad

y el apoyo a la economía generadora de empleo queremos que la fiscalidad vasca tienda a la convergencia fiscal en europa y que permita adaptarse a la economía

incluyendo los criterios también medioambientales y esa es nuestra voluntad y ese es nuestro compromiso de revisión fiscal o de reforma fiscal primando la evaluación de los resultados y el impacto de las medidas implantadas a partir del dos mil diecinueve con respecto a la reforma que hicimos y que acordamos en dos mil dieciocho

como un instrumento de impulso a la demanda agregada de la economía y la financiación de las políticas públicas realizar ahora una reforma fiscal en euskadi de forma urgente como ustedes plantean orientada a subir impuestos puede tener y ustedes lo saben un impacto negativo en la demanda agregada en la renta y en el empleo en euskadi lo que puede conllevar un retraso en la salida de la crisis que creo que es lo que nadie queremos por tanto esa revisión de la fiscalidad vasca podrá materializarse cuando las circunstancias económicas mejoren y permitan ese debate sosegado que esperemos que sea cuanto antes el más interesado en salir de la crisis cuanto antes el mantenimiento y el refuerzo de las políticas públicas tratando de reducir desigualdades que pudiera generar esta crisis sanitaria contando con la suficiencia de recursos económicos sin duda es el propio gobierno vasco el escenario de los ingresos es complicado e incierto y debe gestionarse con rigor y con responsabilidad porque efectivamente la deuda

y en base a ese principio inexorable se meterá la deuda necesaria justificada analizada programada y siempre actualizada

no queremos que la deuda de hoy sea una rémora para el avance de la sociedad vasca en el futuro por eso principios como el de la prudencia en el endeudamiento la suficiencia de recursos para resistir los peores momentos de la crisis sanitaria y superada la pandemia poder reactivar la economía y el empleo así como invertir en cohesión social

punto que planteaba elkarrekin podemos izquierda unida hacer uso de los mecanismos fiscales del parlamento aprobando

no nos parece un recurso al que tengamos que llegar en estos momentos y así lo expresamos también los socialistas cuando elkarrekin podemos trajo

sobre ingresos adicionales para la hacienda general del país vasco mediante recargos sobre diversos y puestos forales

que fue rechazada por el parlamento los socialistas vascos nos mantenemos en la convicción de que la fiscalidad es una herramienta

para construir un país más justo y solidario un instrumento que es necesario para progresar como sociedad para mantener los servicios y las prestaciones públicas y que debe tener un objetivo fundamental que es configurar un sistema equitativo progresivo solidario suficiente y eficiente

equilibrio entre ingresos y los gastos y tiene que contribuir a generar riqueza a la competitividad del tejido productivo y a la creación de empleo

en el año dos mil trece y la de dos mil dieciocho y creemos que debe responder a cualquier modificación del sistema tributario que se lleve a cabo

inédita y excepcional pero poco o más bien nada tiene que ver con la situación

de mil novecientos ochenta y tres que fue cuando se instalaron principalmente los recargos y que hay que tener en cuenta también que en estos momentos las respuestas se está dando a nivel europeo y a nivel estatal cosa que en aquel momento no se dio por lo tanto seguimos contando con herramientas de autogobierno

y que ponen en funcionamiento ese autogobierno y no ha hecho usted alusión al fraude fiscal y a nosotros nos parece a los socialistas vascos nos parece que es un elemento también muy importante

fiscal los objetivos del gasto presupuestario para dos mil veintiuno están claros por parte del gobierno conocemos las necesidades y tenemos los instrumentos económicos y financieros

de las políticas públicas con garantía de seguridad y así podremos impulsar el crecimiento económico y ejercer las acciones precisas de la cohesión social y territorial para euskadi

se insta al gobierno vasco a elaborar los presupuestos del dos mil veintiuno con carácter expansivo yo de verdad no sé si no ha quedado claro pero

que aun con la situación económica y social consecuencia de la pandemia se propondrán unos presupuestos valientes sin recortes y expansivos unos presupuestos sin recortes en salud educación y protección social apostando por las políticas sociales

y no hay mayor aval que la experiencia la trayectoria y el análisis de los presupuestos anteriores donde las partidas destinadas a gasto social siempre han ido incrementando no sé señor soto qué no entiende de esto que nuestros presupuestos sean más progresistas y sociales que los que habéis presentado vosotros en el estado

ondo saltzen badira ere sabemos que serán tiempos difíciles

con el que se trabaja en el departamento saldremos adelante y sí nos endeudaremos

pero para lograr este objetivo no podemos pasar por alto el acuerdo histórico de la comisión mixta del concierto económico

y sí son tasas de referencia señor soto que hemos tenido que negociar porque la ley de estabilidad que su gobierno nos exige hemos tenido que readaptarla que por cierto enhorabuena que el otro día se ha reconocido como parte de un gobierno

este acuerdo es un hito muy importante que reconoce que las diputaciones forales tienen la potestad tributaria en los territorios históricos el concierto económico supone un nivel de autogobierno en materia económica que requiere de respuestas adaptadas a la realidad vasca y así ha sido también en esta ocasión pero nos llama la atención la postura de eh bildu al respecto más concretamente la del señor rodriguez quien dijo y leo literalmente aunque hoy lo ha vuelto a decir nosotros celebramos un acuerdo

y que daba la posibilidad de que nos endeudáramos única y exclusivamente como he dicho antes en función de nuestra situación financiera

por qué este gobierno no defendió ese acuerdo de euskal herria bildu que qué duda cabe era muchísimo más beneficioso que este al que ustedes han accedido

solo recordaré que horas después de su firma el gobierno español salió a desacreditarlo con lo que igual birria

y segundo porque el pnv el veinte de mayo ya acordó con el gobierno español disponer de un porcentaje de déficit sobre el pib para compensar la caída de recaudación

con lo que nosotros no necesitamos de ningún acuerdo de eh bildu para lograr nuestros objetivos eh bildu es una recién llegada a la política española

y ese mismo tiempo llevamos escuchando sus descalificaciones según vosotros el pnv se vendía por un plato de lentejas

podíamos decirles lo mismo ahora que sabemos que bildu apoyará los presupuestos de sánchez

a vuestros descalificativos os respondemos con nuestro aplauso así que aunque tarde bienvenidos

porque a euskadi le irá mejor el representante de eh bildu también indicaba

que es qué duda cabe bastante más solvente que la del ebro para abajo eskerrik asko porque con vuestras palabras estáis reconociendo la buena gestión del gobierno siguiendo con de la moción de elkarrekin podemos nos encontramos con un segundo punto con la necesidad de abordar

el señor gordillo ha indicado lo que no me cuadra mucho es que propongan

una subida puntual de impuestos y en euskadi una profunda reforma fiscal y me remito a vuestra rueda de prensa del lunes y las propuestas presentadas en juntas generales e intentar hacer una breve comparativa en irpf entre otras cuestiones en españa proponéis una subida del dos por ciento en irpf

no vamos a pagar mucha parte de la deuda cuando esta medida solo afecta al cero coma ocho por ciento de los contribuyentes

en euskadi el tipo máximo es un cuarenta y nueve por ciento y en madrid por ejemplo un cuarenta y tres coma cinco

por tanto por qué queréis subir en euskadi el tipo máximo al cincuenta y uno y por qué no

os recuerdo que euskadi es la comunidad autónoma más favorable para las rentas medias y la más desfavorable tras navarra

subida sobre patrimonio en españa y en euskadi pero claro

el impacto recaudatorio es muy diferente y a su vez muy reducido véase la no tributación en madrid por este impuesto

la económica y la generada cuando este impuesto coexiste con el impuesto sobre sucesiones y donaciones

un gravamen de patrimonio y sucesiones con tipos mucho más elevados punto para la reflexión

es esto progresividad cuando las rentas medias bajas son quienes compran este tipo de vehículos ya que su poder adquisitivo no alcanza para la compra de otro tipo de vehículos como híbridos o eléctricos eta azkenik sozietatean zerga impuesto sobre sociedades

en euskadi ya llevamos aplicándola unos años pero no solo eso que en vuestra profunda reforma fiscal

por qué esta diferencia entre territorios aquí tributación mínima y además superar a la que ya tenemos y en españa no proponéis ni siquiera que haya tributación mínima por favor un poco de coherencia

armonización en qué en el tipo sí pero no en la tributación mínima por cierto que el tipo general del is aquí es superior a la media de tipo general la ue veintiocho vale que a dos mil diecinueve era del veintiuno coma siete

con territorio común nosotros estaremos coordinados entre los tres territorios históricos que para eso tenemos el oct y buscaremos estar alineados con europa

y una cosa le digo armonización no es sinónimo de uniformización es curioso también que en todas estas medidas

españa está entre los países que han reducido su presión fiscal global en los últimos doce años y en el is en el impuesto de sociedades perdón su reducción es superior a la de euskadi

el cual ha ido incrementando en los últimos diez años en seis puntos mientras que en españa solo se ha incrementado tres coma cinco

las reformas se tienen que hacer desde un debate serio profundo y sosegado

la recuperación económica en curso aún presenta evidentes síntomas de fragilidad y se encuentra sometida a considerables riesgos a la baja que no aconsejan un aumento generalizado de la presión fiscal en estos momentos por eso posiblemente hubiera sido preferible retrasar la introducción de alguno de ellos hasta que nuestra recuperación económica fuera más robusta

por tanto nos sorprende que en euskadi veáis necesaria una revisión fiscal urgente y en españa no

es que en la presentación de los presupuestos generales del estado para dos mil veintiuno el gobierno del que sois parte

la actual crisis sanitaria y recuperar la estabilidad económica me podría explicar señor soto la diferencia de las urgencias por qué aquí es urgente una reforma fiscal ya y en territorio común no una reflexión que también traslado a eh bildu

jugarán igual no evidentemente no porque mientas allí en madrid o en navarra con unos presupuestos menos sociales y progresistas que los que tenemos en euskadi os ofrecéis a colaborar y a acordar aquí en euskadi solo tenemos zancadillas y portazos

sin dar una oportunidad al diálogo y sin ver los números que insisto son más progresistas y sociales en madrid tampoco parece que les haya hecho falta conocer en detalle las cuentas públicas porque la respuesta estaba clara y la escenificación muy bien planificada

sé que usted es de ciudadanos pero en cualquier caso le tengo que hacer mención a alguna de las herencias que nos ha dejado el gobierno de rajoy para empezar cuarenta subidas de impuestos eso sí no para

ni tampoco las grandes corporaciones sino para las clases menos pudientes

por cierto esa que también se quiere poner en marcha en gipuzkoa amnistía fiscal por otro lado la deuda de la que usted hablaba

parece mentira usted ponga ese condicionante aquí encima de la mesa cuando

herencia del señor rajoy y de su gobierno la situación en la que nos encontramos en relación con la deuda y aquí sí en euskadi estamos en disposición de aumentar la duda más allá

las diferencias que existen que son bastante amplias por otro lado usted habla que por aumentar

no aumenta la recaudación sí

nosotros aumentamos el nivel de gasto público aumenta la capacidad de recaudación porque es un efecto multiplicador se lo he comentado en la anterior intervención en la medida en que se aumenta el gasto público existen salarios por ponerle un ejemplo concreto existen personas

pública existe la opción de recabar ingresos mayores mediante ese aumento de gasto además de que el liderazgo desde la administración de la inversión pública permite que aumente la capacidad productiva del país y por tanto existe más capacidad de recaudación lo que desde luego no

afirmar que en la medida en que no aumentamos los impuestos la capacidad del ahorro estimula la inversión productiva del país no se da esa realidad cuando

de cara a que el ahorro incentive la inversión productiva del país no aumenta la recaudación ni tampoco aumenta la capacidad productiva o la inversión productiva porque ese ahorro por lo general suele estar ligado a intereses económicos ligados al mundo financiero y al mercado de valores que es básicamente donde nosotros ponemos

en su apartado fundamental aborda una bajada de tipos para los tramos que menos disponen en este país

que menos ingresos disponen pero a su vez acompañada de aumentos para las rentas más altas y también en el impuesto de sociedades por tanto no entiendo muy bien porqué habla de que nosotros en nuestras reformas fiscales nunca contemplamos bajadas impositivas a quienes menos disponen si es que lo hemos hecho y hace pocos días ha hablado de otras cuestiones en relación

en fin no es nada que nos trajese el franquismo todas las capitales europeas están abordando la regulación de los alquileres en zonas tensionada no sé usted de dónde se saca que eso es algo

del franquismo entiendo que a usted igual lo que le gusta más es la ley del suelo que de hecho nos llevó a la crisis financiera de dos mil ocho planteada también por cierto por el partido popular su socio

tengan tan claro el horizonte que tienen respecto a la política fiscal porque usted ha hecho mención a las reformas fiscales a las dos últimas reformas fiscales la de dos mil trece y la de dos mil dieciocho y ambas planteaban rebajas en el tipo impositivo del impuesto de sociedades sí sí sí sí ambas ambas lo planteaban de hecho existe una imagen muy ilustrativa de ello

el partido popular y el pnv esa rebaja impositiva con la representante del partido socialista viéndolas venir por tanto sí que creemos que en ese sentido no tienen ustedes muy claro hacia dónde quieren ir en relación con la política fiscal y si no acláremelo porque también hablan de racionalizar el gasto

al gobierno central solicitando aumentos

y en relación con la reforma fiscal en el estado que mencionaba la representante del pnv

una reforma fiscal mucho más ambiciosa de la que se ha planteado pero somos

y también de nuestra presencia en el gobierno central y de las limitaciones que eso supone para alcanzar los objetivos políticos que nosotros como formación tenemos que aquí no podamos hacer exactamente lo mismo que hacemos allí que es impulsar de cara a alcanzar los horizontes

desde nuestro parecer son los más adecuados por tanto no creo que

hay que pelear más allá de lo posible para conseguir los horizontes que nos planteamos

el espejo donde nos tengamos que mirar y como no tengo más tiempo

que qué es el neoliberalismo que nos escucha hablar permanentemente de él pero que nadie hasta el momento no ha acertado

su intervención es una buena síntesis de lo es y son las políticas neoliberales

recortar servicios públicos recortar servicios básicos

para que puedan hacer digamos negocio y extraer beneficios de lo que deberían de ser como digo servicios públicos

la sanidad mercantilizar el cuidado de nuestros mayores mercantilizar en definitiva todas y cada una de las facetas de la vida

bajar los impuestos a los ricos a los ricos y si acaso subírselos a los pobres vía impuestos indirectos todo eso es

pero socialismo para los ricos porque a los neoliberales a ustedes les sobra el estado salvo cuando se trata de rescatar a los de arriba

las crisis que esos de arriba generan y contribuyen

insistía y decía que no es momento de subir impuestos porque esto perjudicaría la recuperación económica

los impuestos a todo el mundo no no no no si es muy fácil de entender estamos hablando de subir los impuestos a aquellos que más tienen que tienen de sobra y que no están utilizando eso que tienen de sobra para invertir y a aquellas empresas que están obteniendo beneficios como he dicho antes

obscenos en la que puede terminar siendo la mayor crisis económica y social de las últimas décadas estamos hablando de subir impuestos a esos y solo a esos para que de una vez por todas

que es lo que le suele gustar decir que arrimen el hombro que se solidaricen y que contribuyan a pagar si quiera parte si quiera parte de esta crisis

hay una serie de políticas neoliberales que durante décadas han arrasado con la sanidad con la educación etcétera etcétera y de aquellos polvos estos lodos

la representante del pnv dice que no entiende porqué seguimos preguntando insistiendo inquiriendo para que los presupuestos del año que viene sean expansivos para que no tengan recortes

que estos presupuestos van a ser expansivos ya hemos dicho que no va a haber recortes por qué seguís insistiendo y preguntando no lo sé porque igual es exactamente

todos y cada uno de los últimos largos años y porque durante todos y cada uno de esos últimos largos años sí ha habido recortes mire le voy a poner un ejemplo que viene a cuento por la situación que estamos padeciendo estos últimos meses en los últimos diez años el gobierno sus políticas

de las camas de hospital en diez años y ahora como he dicho antes pagamos las consecuencias decía que quizá birria es no el acuerdo que alcanzaron ustedes en la comisión mixta del concierto económico sino el que alcanzó euskal herria bildu con el gobierno español

o si va a ser incumplido digo que de incumplimiento de acuerdos algo ustedes hay que reconocerles eso sí saben porque bueno teniendo en cuenta que el estatuto de gernika ese acuerdo que siempre reivindica

y permanece incumplido entiendo que usted de eso y ustedes de eso

que ahora les imitemos en madrid y que vayamos a madrid a hacer las políticas del pnv mire yo le digo una cosa no se equivoque no se equivoque porque vosotras

y vacaciones fiscales nosotros vamos a madrid a arrancar derechos sociales y laborales

durante décadas a sostener el régimen en beneficio de unos poquitos de los vuestros nosotros vamos a madrid a tumbar definitivamente ese régimen en beneficio

a diferencia de lo que ustedes hacen otras veces yo he venido aquí a hablar de su libro de su pnl en este caso moción de las propuestas que hace y tal a mí estos líos que hay aquí entre una bancada y otra a ver quién consigue ser más nacionalista que el otro quién hace más historias que el otro quién es más triguero que el otro pues mire esto es una cosa que no debe a nosotros ocuparnos me divierto mucho

que esto tenemos que analizarlo con la seriedad que merece vamos a ver es que la propuesta que usted hace no deja de ser

va a solucionar todos los problemas la deuda lo arregla todo

como el neoliberalismo soy yo pues imagino que lo que quería decir es que el neoliberalismo es el mal

las privatizaciones confundiendo de manera arbitraria

pero una cosa es la contratación pública la prestación del servicio directamente por parte de las me encantaría tener un debate sobre esto con más tiempo

porque son típicos conceptos que aquí salen mucho le faltado el de la soberanía fiscal

de un lado o de otro mire yo en serio el tema

de la pnl o de la moción esta que ya les adelanto como decía antes que nosotros votaremos en contra es que no responde a lo que debe ser un presupuesto ni a lo que debe ser una política económica en una situación como la actual el hacer una política económica

un intervencionismo superior en la economía con un aumento de la deuda con un gasto que no se va a corresponder con unos ingresos a largo plazo para recuperar es que eso no hay por dónde cogerlo vamos sinceramente creo de verdad sinceramente que es que eso no nos va a llevar a ningún buen sitio esas medidas que usted propone no son buenas para euskadi no son buenas para españa nosotros en eso nos vamos a oponer frontalmente me decía usted a mí que no es que se le suben siempre los impuestos a las grandes corporaciones y tal o perdón que se les baja a las grandes corporaciones se les suben es que es

pues es que tiene que hacer una reforma pero a fondo de lo que es su estructura administrativa tiene que hacer una reforma a fondo de sus procesos de contratación pública tiene que hacer una reforma a fondo del mercado laboral tiene que hacer una reforma a fondo

y cuando hablamos de reformas también pues de las políticas en el fondo de incentivos pues aquí es donde usted

la competencia que usted la ha denigrado hace un momento la competitividad y tal mire la competencia es muy positiva para el consumidor una competencia bien entendida es muy positiva para el consumidor porque impide que los incumbentes y las grandes empresas abusen de su posición de dominio eso es una cosa que está clara

tiene demostrado que aquellos países donde hay unas políticas de competencia realmente desarrolladas pues hay un mayor desarrollo bueno la economía sube

esta receta que usted ha contado aquí me parece maravillosa el aumento del gasto público aumenta la recaudación hombre claro pero no en la misma proporción dice no es que el aumento del gasto público oiga claro

y a ver qué pasa algunas experiencias república de weimar tal pero oiga

yo por eso realmente creo creo que en estas cuestiones debemos de verdad ser serios y sobre todo mandar un mensaje y mandar un mensaje serio de que existen medidas además para poder poner en marcha pues todo lo que tiene que ser la recuperación de la economía y del empleo

el tema este del neoliberalismo y del ordoliberalismo mire el ordoliberalismo que es el modelo económico que existe hoy en día en europa es un modelo que admite

con políticas sociales cosa que sí le gusta siempre y cuando las controlen ustedes con libre competencia y que haya unas autoridades totalmente independientes que lo controlen

realmente interesantes por eso digo que demonizan ustedes a la empresa demonizan ustedes al empresario demonizan ustedes a cualquier tipo de intento de dinamizar el mercado

para poder financiar todas las políticas sociales que en eso sí que podemos estar de acuerdo muchas gracias eskerrik asko gordillo jauna euskal sozialistak corcuera andrea zurea da hitza

gracias presidenta bien sobre los presupuestos

dejar bien claro que además se ha dicho públicamente

y para la transformación económica y social de euskadi que no se van a contemplar recortes en las políticas públicas que se descarta por completo la austeridad y donde se van a abordar los grandes retos de la transformación energética de la transformación digital y además se va a reforzar la resiliencia de nuestro estado de bienestar

por tanto teniendo como base esta cuestión hay quien nos decía por parte del señor soto que aquí se habían dicho muchas palabras vacías no bueno pues ustedes hacen brindis al sol mire nos ha

con traernos una proposición de ley de recargos ya le he dicho mírese la que trajo su compañero porque ya estaba debatida

porque no es algo novedoso que veamos en esta cámara

oiga que ustedes votaron los presupuestos de dos mil veinte que salieron con el voto de elkarrekin podemos no con el de izquierda unida con el de elkarrekin podemos por lo tanto

me descoloca un poco la situación que nos ha venido usted a contar hoy aquí decía no no es que

oiga que no ya le voy a pasar un papelito porque lo traje aquí y no es de esos

reciclado que le va a dejar yo creo que las cosas más claras

subir el tipo efectivo del impuesto de sociedades se quitaron deducciones exenciones por lo tanto no diga usted cosas que no son

no consta no está estaba en su enmienda pero no está en la transacción bueno por el acuerdo hay que dejar cosas en la gatera pues igual pero claro luego no nos dé lecciones de cómo acordar

esos pelos en la gatera luego no puede incidir decía usted

para endeudarnos según nuestra capacidad no queremos subordinación no queremos sometimiento a madrid y a europa y si realmente llegamos a la soberanía a europa tampoco

en fin yo creo que hay que darse un poquito un baño de realidad como poco un baño

y cómo son las relaciones económicas y las relaciones políticas al menos en europa

decía usted no no las subidas para los que realmente tienen capacidad económica y ganan mucho y yo me hago un planteamiento por qué nunca bildu en las últimas negociaciones presupuestarias que se dedicaban al tema del gasto e intentar incrementar el gasto en ciertas partidas digamos sociales

sus prioridades por qué nunca habló del tema de los ingresos las últimas desde luego no fueron ni las del diecinueve ni para los presupuestos

no fueron por ahí las cuestiones que bildu planteaba en la negociación presupuestaria y por lo tanto si tan importantes son caramba cuando llega el momento de negociar hagámoslas valer

yo lo que espero de verdad es que este debate

para aclarar posiciones para retomar dónde estamos cada cual en estas circunstancias novedosas y poder afrontar el debate presupuestario

posiciones y margen no de negociación espero eso porque si este debate lo que ha servido es para decir qué es lo que tenemos cada uno y hasta aquí hemos llegado y este es el margen que tenemos que es ninguno pues bueno

la senda del desapego para unos futuros presupuestos de dos mil veintiuno en todo caso la posición desde

presupuestaria desde luego sin vetos sin exclusiones sin apriorismos y desde luego con el mejor de los ánimos no vamos a ahorrar ningún esfuerzo por llegar

pero gracias a lo que el pnv durante años y años ha hecho tenemos estas cotas de autogobierno económico financiero unas cuentas saneadas con margen

y un relevante músculo en sanidad educación y protección social y no es una impresión mía las agencias de calificación nos posicionan con un sobresaliente un rating a y en la emisión de bonos publicado estos días atrás la demanda con mucha presencia de inversores internacionales ha sido muy superior

todo ello servirá para cumplir con nuestro compromiso de presentar unos presupuestos valientes sin recortes y expansivos si bien debemos seguir trabajando para fortalecer nuestro sistema y desarrollarlo

porque trabajamos por el bien común de nuestra sociedad a la que también tenemos que agradecer el enorme esfuerzo que lleva realizando en estos últimos meses tan complicados esfuerzo

que esa reforma fiscal pueda ser revisada una vez veamos los resultados en la reactivación económica y social

o los presupuestos valientes de dos mil veintiuno en los que el gobierno vasco está actualmente trabajando

que en numerosas ocasiones el consejo de la unión europea ha estimado que los aumentos en la imposición directa disminuyen las posibilidades efectivas de crecimiento económico y esto es lo que consideramos una subida de impuestos generaría empobrecimiento y podría poner en peligro la demanda que es lo contrario a lo que queremos conseguir

y cobertura social por tanto presupuestos valientes y sin recortes sí por supuesto reforma fiscal también pero no ahora queremos un modelo de impuestos justo progresivo y equitativo una fiscalidad que lograse una euskadi más solidaria y justa

de la fiscalidad si bien esta revisión debe tener en cuenta la nueva realidad económica surgida tras la crisis del covid diecinueve la posible evolución en materia de empleo las capacidades y competitividad de nuestras empresas así como las aportaciones extraordinarias que estén previstas por el gobierno de españa y en la proporción que corresponda de la unión europea

adecuada a la nueva realidad y orientada a una mayor progresividad para el reforzamiento de los servicios públicos y el apoyo a la economía generadora de empleo

y que permita adaptarse a la economía y a los retos emergentes incluyendo los criterios medio ambientales

se han ido comentando en las intervenciones anteriores rodriguez jauna

vuestro voto favorable sin todavía ver los números de los presupuestos generales de euskadi ahí ahí qué hay qué hay detrás de ese voto favorable qué habéis conseguido vosotros con vuestro voto favorable nosotros ya sabemos lo que hemos conseguido con nuestro voto favorable

espero que sea en beneficio que lo que consigáis sea en beneficio de toda la sociedad vasca

en cuanto a predisposición de acordar aquí y allí y tal

para acordar los presupuestos de euskadi que tras intensas reuniones al final

entendemos que no estemos de acuerdo en todo si es normal tenemos modelos distintos entiendo que eh bildu tampoco estará de acuerdo con todo lo que dice el presupuesto estatal no por ejemplo el incremento a la partida de la casa real

pues eso un modelo distinto al que no tenéis problemas en aceptar eta hemen zer zergatik ez

kalean uso etxean otso respecto a la transaccional he leído una frase sobre que queréis equiparar la carga de los rendimientos de capital a la de rentas de trabajo lo que sí que habría que mirar es el origen de esas rentas porque los rendimientos del capital mobiliario

la no exención al cien por ciento que propone el grupo elkarrekin podemos pues la doble imposición se incrementa por tanto para equiparar hay que tener una visión global en conjunto

si lo hiciéramos nosotros el grito en el cielo pero es que además la señora gorrotxategi que nos decía que el pnv tenía dos caras pues pues con esto lo que confirmamos que dos caras tenéis vosotros legebiltzarkideok eredu politiko ezberdina daukagu

on bat eliminando las barreras que ha creado el tren con el paso del tiempo instalando la doble vía soterrando

urgente la opción que finalmente se escogió para donostia seguramente

en gran parte o se estaba construyendo hasta la aparición del famoso socavón el mes de junio

ez zuelako entre junio y el siete de octubre lo que tenemos de forma pública es un túnel del tiempo en el que no sabemos en qué se estuvo

sabemos en las últimas semanas que se rescinde el contrato del tramo miraconcha easo debido al importante incremento presupuestario y que se tendrá que licitar de nuevo

beharra baina guk eta esango nuke hiritarrak orokorrean informazio eta datu guztiak behar ditugu antes de iniciar un nuevo proceso de licitación y adjudicación

el alcance de las características del terreno que han impedido el desarrollo del proyecto de acuerdo al proyecto constructivo

constructivo inicial seguramente algunos datos

unai fernandez de betoño por tanto como es una información aportada por ellos

no voy a entrar en ello eta horrexegatik datu ezberdin eta balorazio ezberdin

por qué no se incorporaron los estudios de terrenos suficientes y correctos por qué no se determinaron las alternativas tan reales como que a escasos metros del mar pudieran existir terrenos arenosos y con agua y por qué no se establecieron escenarios alternativos sabemos también que el contrato

de más del quince por ciento este tema no es exclusivo de este proyecto por desgracia pasa con demasiada frecuencia en la contratación pública adjudicación con bajada de costes

tener son consecuencias en las condiciones laborales de los trabajadores de dichas obras y también por supuesto la finalización con

lehen por otro lado

se han producido infinitas quejas y protestas por la falta de seguridad laboral

subcontratas ela llegó a interponer doce denuncias a la inspección de trabajo y en los juzgados se denunciaron jornadas de más de diecinueve horas diarias y el tribunal superior de justicia del país vasco

a la vida y a la integridad física de los operarios que realizaban el transporte y el movimiento de tierras en las obras del topo esto demuestra y es lo que pretendemos también además con nuestra iniciativa que

ni el gobierno vasco no cumplieron con su labor de vigilancia con respecto a la seguridad y respeto a los derechos de los trabajadores y es una muestra más de un modelo que favorece los beneficios

a base de precarizar las condiciones de trabajo de los trabajadores eta hau da hain zuzen ere eskatzen duguna hori betetzea kontratu

gracias lo dije hace dos semanas

que gipuzkoa necesita como agua de mayo poner en marcha un servicio de metro que dé servicio y conexión integral desde zumaia a zarautz pasando por san sebastián y llegando hasta hendaya

son vascos de primera parece que para los señores de bildu la cuarta línea o la quinta línea de metro de

no lo es según ustedes acaso los vizcaínos merecen mejores conexiones que los guipuzcoanos ya me aclararán ustedes esto

en el último pleno de control que para los guipuzcoanos era mejor invertir en más líneas de autobús que en vez de una línea de metro y me da la sensación que se aplican distintas teorías según los territorios es decir la ideología verde vale para vizcaya

que me extraña y me da la sensación de que se les está pegando aquello que les ha pasado durante años a los señores del pnv

decir ciertas cosas pero no quisiera entrar en detalle pero por ejemplo qué ha pasado con los fondos europeos

millónes de euros que van a llegar aquí al país vasco pues por ejemplo san sebastián solo destinarían cincuenta y cinco millónes

territorio al que abocan a perder todos los habitantes de las zonas rurales porque no tienen ni tan siquiera un centro de salud o un turno de atención semanal en el pueblo o una ambulancia que en caso de urgencia

pero al margen de la gestión entre territorios que llevan los gobiernos del pnv desde hace años

llevamos más de treinta y uno años defendiendo la necesidad de una línea de metro que una a los guipuzcoanos y hoy estamos de acuerdo en hacer una crítica en la gestión de esas obras

sabemos cuál es nuestro objetivo lo voy a repetir por si no ha quedado claro

una línea de metro a la altura de una provincia de primera y la pasante de la que se está hablando hoy aquí

ello no quita que no estemos vigilantes con la gestión de dicho proyecto

para que abordar un túnel bajo una de las zonas con mayor concentración de habitantes por metro cuadrado

que no pasara por la cabeza de los que hicieron el proyecto que podía haber filtraciones de agua y arena que estamos en una zona con agua y con arena

esta situación vamos a ver la composición de la plataforma no responde a criterios rectilíneos pueden existir diferentes composiciones a nivel de material al mismo nivel

lo saben y saben a qué se exponen los arquitectos supongo que también lo sabían con las mediciones que habían tomado

creer que ustedes los señores del departamento de transportes

es que siempre estamos con lo mismo ya nunca pasa nada hasta que pasa

una vez que ya hay que rehacer el proyecto cosa que es irremediable háganlo

la intervención a realizar y no les voy a negar que no genere cierta suspicacia en mi grupo en mi equipo

anunciado por el señor arriola en el pleno de control anterior incluso en prensa

seguimos apoyando un proyecto que cambiará y enriquecerá de manera

proyecto que se va a retomar esta vez esperemos que así sea con las medidas necesarias para que no se repitan incidentes

hay que pensar y me pongo en el lugar de los vecinos que antes de que ocurra una desgracia mayor lo que tenemos entre manos es importante

puede acarrear importantes daños materiales pero incluso personales así que por favor pónganse las pilas y tampoco está de más que garanticemos los nuevos pliegos las condiciones

de quienes van a proceder a los trabajos a la mano de obra aseguramos

por lo que pueda pasar y tienen que tener en cuenta los problemas que se han venido ocasionando a los vecinos durante todo este tiempo

si no lo han hecho pueden preguntarme que yo les explico

pero quiero decirles a esos vecinos que sé que esas obras que ahora están sufriendo traerán algo mucho mejor para san sebastián también lo sé pero

de los obreros y por lo anteriormente expuesto nosotros hemos transaccionado una enmienda

con otros grupos con el pse y el pnv y creemos que es importante

para seguir con las obras y con el desarrollo de una conexión integral

podemos y ante las reiteraciones del señor martínez de sus deseos de tener información yo lo que sí le recomendaría

realizaran algún tipo de pregunta al señor consejero en relación a este proyecto porque hasta la fecha no han realizado absolutamente

si lo hubieran hecho es muy probable que hubieran tenido respuestas que nos hubieran evitado estar hoy aquí perdiendo el tiempo hablando debatiendo sobre cuestiones que ya se están realizando

que ustedes solicitan ya lo dijo el señor consejero en la fase de proyectos

soterrada cincuenta perfiles de geofísica concretamente estudios también de tomografía

utilizado en un ambiente urbano teniendo en cuenta que el ratio habitual

el número entendido como ratio habitual debería haber sido de cinco sondeos

siete veces más en total y más de cuatro veces más en cuanto a los nuevos sondeos

que no hace falta ningún tipo de auditoria en cuanto a la situación actual reitero actual de algunas circunstancias o cuestiones que usted apunta señor martínez

segundo de la inclusión en los nuevos pliegos de cláusulas sociales le diré que los contratos de obra que licita el ente público red ferroviaria

nueve barra dos mil diecisiete de ocho de noviembre de contratos de sector público por tanto incorporan todas las cláusulas sociales

que establece dicha ley y con los que por supuesto este gobierno es perfectamente estrictos además se han ido incorporando condiciones de orden social ambiental etcétera que afectan a requisitos de solvencia no se los voy a decir porque entiendo que si usted realizara la pregunta correspondiente o solicitara la información correspondiente ahí la

evidentemente se exige siempre cumplir con las disposiciones legales reglamentarias convencionales vigentes en materia laboral de seguridad social y de seguridad y salud en el trabajo además existe la posibilidad de exigir y

los datos y documentos relativos a las condiciones laborales de cada una de las personas trabajadoras datos que entre otras cuestiones deben de aportarse

el salario recogido en el convenio colectivo sin que en ningún caso el salario a abonar pueda

que ustedes creo que las deberían de saber de sobra y que en el caso de la pasante ferroviaria de donostia

esas condiciones no solo están adscritas sino que además exigidas en una mayor medida y le puedo asegurar puede realizar la solicitud de información correspondiente que ese es estricto por parte de la dirección de obra y por parte del gobierno en la solicitud de esa información y del control del desarrollo técnico

a la inclusión en los nuevos pliegos de mecanismos de control en fin creo que con la entrada en vigor de la ley nueve barra dos mil diecisiete

las incorpora sobradamente y por supuesto tampoco las voy a repetir porque entiendo

saber de sobra por tanto además de eso indudablemente existe la facultad que le corresponde a la inspección de trabajo y seguridad social

que han redactado el correspondiente proyecto y que evidentemente eso de alguna manera también estará a disposición de los

minimizar las afecciones y las molestias de los vecinos permítame que le diga que hay varias han sido las

de las empresas que han obtenido la licitación de dichas obras en primer lugar

ubicada en la estación de amara encargada de recoger y coordinar las quejas y reclamaciones relacionadas con las obras además de los comunicadores de calle puestos por la propia empresa

informes acústicos que por cierto para que tengan en cuenta un dato en junio del dos mil dieciocho se evaluó inicialmente la situación acústica preoperacional de los dieciséis puntos urbanos sensibles en el trazado curiosamente en catorce de esos puntos se sobrepasaron efectivamente los niveles de referencia pero no

por el ruido viario en definitiva creo que todo eso

ya realizando se es exigente también con esas premisas y el gobierno en este sentido creo que está haciendo perfectamente su labor en cualquier caso

que ustedes lo aclararan si verdaderamente ustedes están a favor de ese proyecto o no están a favor de ese proyecto porque creo que también sería bastante esclarecedor

redactada me quede absolutamente ojiplático se lo tengo que reconocer porque así fue con la iniciativa que han presentado hoy solo demuestran una vez más

de este país una vez más a la vez que el gobierno vasco anuncia unos presupuestos más expansivos a pesar de la situación complicada que estamos viviendo

en ninguno de sus ámbitos la forma la que ustedes se utilizan o que ustedes quieren aplicar para superar esa crisis como siempre es la paralización

la rescisión de los contratos de este proyecto estratégico han echado la cuenta piensan que la mejor fórmula es tener que indemnizar a las empresas adjudicatarias como hicieron ustedes con la planta de valorización energética en gipuzkoa que costó a los guipuzcoanos y guipuzcoanas cuarenta y cinco millónes de euros porque a ustedes simplemente aquel proyecto no les gustaba

y no a otros proyectos por qué renuncian a un proyecto que implica también la regeneración por ejemplo de pasaia a través del proyecto de altza galtzaraborda o es que están ustedes de acuerdo única y exclusivamente

no por qué quieren renunciar a que un porcentaje alto más del sesenta por ciento de la población guipuzcoana tenga un medio que le facilite su desplazamiento a su centro de trabajo o su universidad por qué quieren renunciar a un medio más seguro y sostenible

en detrimento al vehículo privado por qué echan tierra constantemente sobre un proyecto que ya está avanzado mientras se dedican a empapelar las paredes de zorroza y rekalde en bilbao

por qué por qué deciden que se debe renunciar a este proyecto y a otros no qué dirían ustedes si otro grupo parlamentario representado en esta cámara

solicitando que se eliminaran las ayudas por ejemplo a determinados colectivos a la cultura

creo que en esta cuestión tenemos que ser muchísimo más serios y muchísimo más responsables todos absolutamente todos efectivamente el gobierno

realizando propuestas que estén debidamente fundamentadas y que no se basen única y exclusivamente en el fácil discurso

no equivoque lo que ustedes dicen que defienden lo llevan denostando durante muchísimo tiempo es lo que generalmente suelen hacer absolutamente con todos los proyectos que impliquen avance y progreso para este país lo hicieron también con el metro de bilbao que ahora ponderan

el problema de transporte que tenía bilbao háganse la misma pregunta veinticinco años después con todo lo que ha supuesto para la movilidad no solo de bilbao

como el metro de bilbao a la que ustedes se oponían frontalmente en palabras del propio portavoz de herri batasuna en aquel momento

de bilbao en fin desde luego que escuchando algunas intervenciones de algunos representantes portavoces de la oposición creo que este gobierno

que los técnicos que han relatado los proyectos este gobierno debería de empezar
muy seriamente encargar la redacción de los mismos a los grupos de la oposición eskerrik asko eskerrik asko andueza jauna euzko abertzaleak berasaluze andrea zurea da hitza

cosas que se han dicho en la tribuna y bueno la señora siempre suelo decir lo mismo pero creo que vas a tener que inventar también la fórmula

en la oposición y también por alguna afirmación que me ha hecho el señor andueza pero es verdad que esas preguntas están hechas pero nosotros hemos estado en contacto

y hemos pedido la información y si evidentemente

bueno en la parte de la información pública de las empresas públicas todavía tenemos mucho que avanzar y creo que esa información debería ser accesible a toda la ciudadanía y si quiere pues le podemos dar también la respuesta vía correo electrónico de la empresa

la representante de nacionalistas vascos porque ustedes la propuesta atzo edo bai atzo andueza

ingurukoa orduan yo no tengo la información suficiente para afirmar que va a ser

el que lo diga pero queremos hacer nuestras afirmaciones y nuestros posicionamientos políticos teniendo toda la información y un análisis de las responsabilidades

utilizado un término parecido en mi primera intervención por tanto queremos que antes de iniciar y que se licite un nuevo proyecto tengamos toda la información sobre el mismo y por eso no hemos entrado

en esta transacción con los partidos que sostienen al gobierno y con pp ciudadanos y no tiene nada que ver y bueno

una coletilla que desde el pnv y el soe se utiliza mucho

tema que euskal herria bildu como es público desde hace mucho tiempo tampoco me parece ningún drama que dos formaciones de izquierdas no tengan la misma posición

en la misma coalición y por tanto no pasa nada no vean fantasmas donde

y mi relación con el señor fernández de betoño va a seguir exactamente

y por último yo creo por algunas de las cosas que se han dicho aquí y por algunas de las cosas que también el consejero de transportes que tiene una responsabilidad mayor que la del señor andueza en este tema

el tono cuando se intentan buscar que desde la oposición se buscan enfrentamientos entre territorios en el apartado de las infraestructuras y es lo que se ha dicho

repasaremos las actas pero se ha dicho y el señor arriola

en el mundo del transporte en euskadi y nuestra posición con este tema

en mi primera intervención queremos la mejor

desde donosti hasta hendaya lo he vuelto a decir que se tiene que

todos los sitios donde técnicamente sea viable la parte de los soterramientos que he citado la liberación de los terrenos que se tiene que hacer especialmente en orereta y en pasaia y también he dicho que esta no era la única alternativa en su día pero que ahora mismo es la que tenemos en marcha y que como va a seguir en marcha nuestra posición de elkarrekin podemos e izquierda unida con esto es que las cosas

hasta ahora y los hechos demuestran que no se han hecho como se deberían de hacer ni en la gestión de la obra ni en la gestión de usted decía de las clausulas sociales bien estarán metidas pero también hay sentencia del tribunal superior de justicia del país vasco que ha condenado

sentido en materia laboral por tanto nuestra posición en esa materia es clara como se va a hacer que se haga bien eskerrik asko

apostamos por una movilidad sostenible la pasante va a quitar de las carreteras y de las calles de gipuzkoa muchos vehículos y apostar por

la movilidad sostenible sacar de las carreteras vehículos

hacer que haya menos ruido en las calles de san sebastián para que la gente pueda utilizar una línea

que le satisfaga y que le pueda hacer desplazarse al trabajo sin tener que utilizar el vehículo particular aparte de como ha dicho la señora del pnv que va muchas posibilidades urbanísticas a san sebastián es bueno para gipuzkoa y de ahí a entrar a explicar por qué hemos presentado una enmienda a la proposición de podemos

simplemente le voy a decir que en esta postura y en muchas no vamos a conseguir centrar o no vamos a conseguir

no podemos coincidir no le moleste simplemente apostamos por el metro de donostialdea y

eskerrik asko mahaiburu andrea mire señor martínez lo que es triste es que desde los grupos que sostenemos al gobierno tengamos que hacer un control a algunos grupos de la oposición porque no hacen su trabajo si usted quiere información lo que tiene que hacer es pedirla simple y llanamente pedirla hacer su trabajo y si pide estoy convencido

lo que no entiendo es para qué quieren una auditoría si ustedes previamente ya tienen sus propias conclusiones redactadas no sé para qué la quieren si ustedes ya sus conclusiones las tienen hechas

de betoño con absoluta sinceridad le digo que ustedes de alguna manera quieren ser

una vez más también lo que no entiendo es por qué es socialmente inaceptable una inversión como la del metro de donostialdea y otras en cambio sí porque ustedes lo deciden

sino de criterio de criterio de oportunidad y sobre todo de criterio a la hora de hacer proyectos que nos permitan avanzar y modernizar las infraestructuras de nuestro país

no lo van a utilizar como no utilizan el metro de bilbao

como siempre la diferencia entre ustedes y nosotros es que ustedes ven gasto nosotros vemos inversión de futuro una inversión que además trae beneficios sociales porque esa cuestión esa vertiente también está analizada y nosotros vemos una inversión que va a posibilitar también la construcción de quinientos viviendas sociales y la generación de más de seis mil quinientos metros cuadrados de espacio público verde

puede ser una inversión social en cuanto a una apuesta por la sostenibilidad por la integración ambiental por la disminución del ruido por apostar por soluciones soterradas por la reducción de emisiones que se estiman de veintitrés mil quinientos toneladas de ce o dos al año o con un ahorro incluso

esa por ejemplo puede ser otra apuesta social mire es una apuesta por la sostenibilidad porque al fin y al cabo es una apuesta por un transporte público eléctrico sin emisiones de ce o dos

porque es el medio de transporte más puntual porque es el que más flexibilidad puede aportar a la hora de incrementar las frecuencias porque esa ampliación permite tener frecuencias

flexibilizarse y adaptarse ante cualquier evento cualquier circunstancia excepcional como por ejemplo esta que estamos padeciendo en la actualidad porque en cuanto a accesibilidad es un transporte público sin barreras para personas con movilidad reducida porque es un transporte también mucho más seguro por las condiciones en las que se desarrolla

para que la ciudadanía viaje de manera mucho más segura por la noche y no quiero entrar en más detalles en fin porque creo que permite el vehículo privado en el centro de donostia san sebastián porque va a permitir la conexión de muchos rincones de gipuzkoa empezando desde eibar y terminando en hendaya de un porcentaje altísimo de la ciudadanía de gipuzkoa porque va a permitir

mucho más barata mucho más eficaz mucho más sostenible a muchos estudiantes a la universidad en donostia exactamente lo mismo con muchos trabajadores y trabajadoras

en esas mismas condiciones en definitiva porque creo que esto trae

muchísimos más beneficios sociales a la ciudadanía que el no por el no

y mucho más allá sí como ustedes han propuesto aquí la rescisión de determinados contratos para que ese dinero que hipotéticamente o que seguro también

gobierno por los efectos que tendrían en cuanto al no cumplimiento de esos contratos tendrían para la ciudadanía por tanto le repito y le reitero que por favor cuando vayan a traer aquí algunas propuestas determinadas una de dos o se las trabajen un poquito más o por favor no caigan

que terminan contradiciendo lo que ustedes en su momento defienden que es el no para el día de mañana